zer el la el la votacion

bozketaren emaitza que las tarjetas hay que meterlas bien bozketaren bozketaren

a ver y ahora funciona verdad que funciona no sabemos

la máquina nunca falla ese es el problema nunca falla

ondo sartuta funciona ahora sí pues entonces funcionaba antes también

sartu txartela no pero espera antes funcionaba antes la tarjeta

ahora funciona la tarjeta bozkatuko dugu berriro

no funciona ahora sí gracias buenos días a todos y a todas presidenta lehendakari consejeros consejera señorías aprobamos un buen dictamen

y hoy tratamos su resolución definitiva en este pleno un dictamen sólido un dictamen sin acritud un dictamen constructivo el texto del dictamen lógicamente está en la documentación del pleno con la descripción de la situación a través de los antecedentes de hecho los hechos probados en relación con las distintas irregularidades en los procesos

y las conclusiones y responsabilidades cuando por parte de la administración las cosas no se hacen bien y se identifican los problemas tenemos la obligación

y este dictamen lo hace con el análisis los hechos las conclusiones y sobre todo con las recomendaciones vuelvo a decir quiere ser un dictamen

en su relación con la administración razón de más para analizar lo que tiene que ver con las malas prácticas o con la concertación ilegal en este caso

en la comisión hemos escuchado declaraciones testimonios y estudiado documentos y mi grupo ha llegado a las conclusiones finales

el pasado veinticinco de junio en la última sesión de la comisión de investigación y que se refleja en este dictamen aprobado por la mayoría de la misma la comisión de investigación del proceso de adjudicación de la prestación de los comedores escolares de gestión directa del gobierno vasco desde el año dos mil tres y responsabilidades políticas derivadas

ante las numerosas alertas que llegaron a este parlamento por ciudadanos privados y por autoridades públicas y tribunales y debe de formar parte de la normalidad

de la administración y sus responsables en cualquier actuación con dinero de los presupuestos generales de la comunidad autónoma mi grupo

de las cuestiones analizadas y en lo constatado por la autoridad vasca de la competencia que luego fue ratificada por el tribunal superior de justicia quedaba acreditada la práctica concertada de reparto de mercado en la prestación de servicios de comedores escolares de gestión directa del gobierno vasco y el refrendo

jurídico administrativo que la administración competente hizo en sucesivos años a esa concertación con la asunción de esa situación de hecho

medidas correctoras y todo indica que un mayor control de la administración y del departamento de educación concretamente en todo el proceso de pliegos de exigencias administrativas el proceso de licitación etcétera hubiera evitado precios por encima de lo normal

la principal consecuencia y motivación de la concertación ilegal entre empresas fue la de alterar los precios del mercado en su propio interés

a esta conclusión llegó la autoridad vasca de la competencia al afirmar que el sistema de adjudicación existente entre dos mil dos y dos mil catorce ha tenido un efecto de mantenimiento de los precios por encima

de los servicios de restauración colectiva a centros públicos de enseñanza con comedores de gestión directa dependientes del departamento de educación cuestión grave y además

que esta actitud concertada ilegalmente ha supuesto de una manera multidireccional también el dictamen en los hechos constatados en lo que se refiere a quebranto económico en la administración y las familias dice que por otra parte esta comisión dirimir si el reparto ilícito del mercado por parte de las empresas adjudicatarias supuso una merma a las familias usuarias del servicio de comedores y o a la ciudadanía vasca en general y a la vista del sobrecoste estimado en el apartado anterior sí se considera acreditado un perjuicio patrimonial a las arcas públicas a la ciudadanía y a las familias usuarias al constatarse que los precios por los que se ofrecían los menús eran más caros de lo que hubieran sido

esa concertación y si hemos detectado esas graves deficiencias e irregularidades el trabajo de la comisión no podía quedarse en una simple descripción de sucesos en unas recomendaciones

planteamientos o conclusiones globales era necesario desde luego concretar afinar detallar más

la presidencia de la comisión y definir mucho mejor de qué se estaba hablando qué se estaba investigando para llegar a las conclusiones

y por ello analizamos elegimos rigurosamente claramente las enmiendas propuestas al dictamen por el grupo elkarrekin podemos

fundamentadas en un estudio detallado de las cuestiones que afectaban a la concertación entre varias empresas para repartirse el mercado y alterar los precios

ilícito esas enmiendas que hoy son el dictamen fijaban de una manera mucho más concreta los perjuicios que la práctica de la concertación ha causado a las arcas públicas a la sociedad y a las familias usuarias por ello

compartimos todas las cuestiones referidas a la concertación ilegal de empresas

a las responsabilidades políticas a las consecuencias de la concertación ilegal desde luego también a lo que tiene que ver con el quebranto económico a la administración a las familias y a la ciudadanía en general esas cuestiones todas ellas

de los hechos constatados también compartimos la mayoría de las recomendaciones que ampliaban y concretaban las referidas en el texto inicial en el borrador de dictamen inicial

me referiré brevemente eran interesantes

que la administración debe de abordar de cara a que cuestiones así no se produzcan y por último también las conclusiones que apoyamos y compartimos contenidas en aquellas enmiendas setenta y dos a setenta y cinco que hoy son las conclusiones

concertación ilegal unida al quebranto económico y a lo que el propio tribunal superior de justicia del país vasco calificó como esto es grave falta de reacción

de consulta o prevención por parte de la administración por parte del departamento de educación en relación con esa práctica hace que sea procedente fijar

también tenemos que decir lógicamente se dice en el dictamen y estamos todos de acuerdo la valoración de que no se ha acreditado que se haya producido colaboración connivencia en relación

sancionadas y los responsables del gobierno vasco en todo ese tiempo

y para que este tipo de malas prácticas que perjudican a la sociedad no se vuelvan a producir es importante seguir las recomendaciones que el dictamen

pleno contempla en relación con cuestiones básicas a la hora de entender a la hora de estudiar de analizar y de organizar y de regular

de comedores escolares es un servicio que forma parte también de la educación es un servicio

a un control mucho más estricto del que ha estado hasta ahora en relación con algunas cuestiones que forman parte de las recomendaciones del dictamen

recomendaciones en cuestión a la gestión descentralizada del servicio recomendaciones sobre el precio del servicio la recomendación sobre la elaboración de los pliegos desde luego sobre los anuncios previos de licitación

en la comisión sobre los tribunales de contratación también

esencial recomendaciones sobre el control a posteriori de los contratos y recomendaciones sobre las sanciones cuestiones claramente descritas y desarrolladas en el texto del dictamen de la misma manera el dictamen se cierra con las conclusiones claras y que

las conclusiones ahí están cuatro conclusiones

cometida por las empresas adjudicatarias del servicio de gestión de los comedores escolares públicos entre dos mil tres y dos mil quince sancionada como infracción muy grave a la ley de defensa de la competencia por la autoridad vasca de la competencia confirmada

queda acreditado como segundo punto de esas conclusiones

de comedores de entre setenta coma ocho y ochenta coma dos millónes de euros entre dos mil tres y dos mil quince de los cuales entre veintiocho coma siete y treinta y tres coma siete millónes se habrían quebrantado al departamento de educación y entre cuarenta y dos coma uno y cuarenta y ocho coma cinco millónes de euros se habrían detraído a las familias o a través de las cuotas de comedor

y la consejería del departamento como responsables de la inacción pasada de la administración ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta en el presente ante el quebranto patrimonial sufrido por la administración y como cuarto punto

de introducir cambios relevantes en el sistema de gestión directa

en la financiación del sistema en los criterios técnicos de los futuros pliegos de contratación o en la necesidad de establecer mecanismos rigurosos de control y seguimiento

unas conclusiones claras que responden a lo investigado por la comisión y que ponen deberes también a la administración

responsabilidades claras en relación con lo sucedido señorías estas son las razones

al grupo parlamentario popular a votar afirmativamente al dictamen de la comisión de investigación que estudiamos en este pleno muchas gracias

gracias presidenta buenos días señoras y señores parlamentarios

señor barrio creo que asistimos aquí a una especie

de debate falso un debate que está sustentado no sé si decir en mentiras desde luego a muchas inexactitudes algunas buscadas y otras

de que durante años haya habido unas prácticas de contratación del servicio de comedor escolar francamente mejorable pero no delictivo como algunos pretenden dejar sentado o insinuar en el dictamen me refiero no tanto en su intervención

y después han querido ajustar las conclusiones a lo que ya tenían previamente establecido y vamos a intentar establecer lo que creemos nosotros que no se corresponde con la verdad

en absoluto que estas prácticas hayan causado perjuicio económico a las familias y quiero empezar por ahí porque cuando la pasada primavera

el partido popular decidió cambiar su posición para dar aire a sospechas infundadas hubo familias que se dirigieron a este grupo parlamentario

es decir desde hace ya muchos años las familias pagan lo mismo con una ligera variación por efecto del ipc nada más por lo tanto no sé

de repente se estima un coste de veinticinco millónes de euros de perjuicio a las familias que no se corresponde con la percepción que las propias familias

en la mano parece que es un dato contrastable en fin esto es así porque entre otras cosas en los concursos ese precio quedaba fijado previamente otra cosa es el precio final del servicio para la administración que es verdad

un perjuicio económico a la administración pero queremos dejarlo claro desde el principio porque ha sido un argumento recurrente en esta legislatura y en la anterior

u ochenta millónes de euros datos que ni siquiera la autoridad de la competencia avala y que no se sustentan en nada concreto más allá de especulaciones de ingeniería

por parte de alguna de las enmiendas así que en primer lugar no ha habido ningún perjuicio económico para las familias que recibían el servicio ni en precio y desde luego ni en calidad tampoco ni en la seguridad alimentaria porque afortunadamente mientras que en algunas otras redes

han ocurrido por desgracia algunos casos de intoxicación alimentaria en todo este periodo no ha habido ni un solo incidente en ningún centro público de la comunidad autónoma que establezca que haya habido ningún caso de intoxicación alimentaria

no hay responsabilidades políticas que establecer sobre un sistema que evidentemente es mejorable pero que respondía y quiero dejarlo claro también a la legalidad del momento y que no puso en peligro ni la salud de los escolares ni la economía de las familias pero esto

lo sabemos porque algunos hemos estado casi dos años en la comisión de investigación y hemos escuchado

nadie ninguno de los consejeros ni de antes ni de ahora

lo que sí hemos escuchado y comprobado documentalmente es que efectivamente los hechos denunciados se realizaron cuando el marco de la competencia era absolutamente distinto al que tenemos ahora es decir no era un criterio que estaba en la administración en aquel momento porque no se había establecido como tal y que las prácticas que hoy se ven como irregulares en su momento

porque la competencia no era algo que se tuviese en cuenta a la hora de elaborar pliegos de condiciones no por esta administración por ninguna pero es falso como se establece en el dictamen

que no se hiciera nada porque también se deja caer que hasta el dos mil doce

de ningún tipo y no es cierto se falta a la verdad nuevamente la consejera celaá explicó cómo quiso cambiarse el modelo durante su gestión

las propias actas de la autoridad vasca de la competencia establecen que en el dos mil diez se puso en marcha una modificación del servicio de adjudicación de comedores escolares aumento del número de lotes para tratar de evitar que las mismas empresas se llevasen los mismos lotes y ese acuerdo inicial fue recurrido por las empresas adjudicatarias al órgano de recursos contractuales de la administración que dio la razón a las empresas y obligó a suspender aquel trámite y volver

un intento serio de modificar el sistema de adjudicación que no pudo hacerse pero no se puede faltar a la verdad y decir que no hubo ninguna intención siquiera de modificar el criterio pero es que además me parece interesante recordar que fue aquel mismo gobierno y no por casualidad el que creó la figura de la autoridad vasca de la competencia con carácter independiente para hacer valer los criterios europeos en este ámbito cuando se producen contratos públicos es decir no es que

voluntad política de un gobierno para crearla y fue esa misma autoridad la que detectó después

de prácticas colusorias prácticas que por cierto nadie discutió en la comisión de investigación porque evidentemente no solo había un informe de la autoridad vasca de la competencia sino una resolución judicial del tribunal superior de justicia del país vasco

la forma de hacerse y atendiendo a una de las reclamaciones iniciales la que por cierto compartimos los socialistas con euskal herria bildu sobre esta cuestión

a la gestión directa por parte de los colegios de las asociaciones de padres

decidan en cada centro si sumarse a esta iniciativa o no hacerlo

esa posibilidad y eso me parece que es una novedad importante pensamos que es falso como ya he señalado que haya perjuicio económico para las familias afirmo que no

el precio que debían pagar por el servicio se fijaba de antemano con independencia del coste que supusiera para la administración pública que es cierto que sí tuvo que asumirlo

se detectó el más mínimo riesgo alimentario

anualmente por estos comedores desde que esto empezó en la época del señor oliveri el señor campos

está claro que fue garantista en lo que interesaba e importaba y creo que es bueno que así fuera a todos ellos garantizar la seguridad alimentaria

de los centros públicos de la comunidad autónoma del país vasco y eso se consiguió plenamente nadie ha sido capaz de discutir ese aspecto

que no me gustaría hacer referencia a un partido pero lo tengo que hacer porque en fin hasta justo antes de las últimas citas electorales

coincidíamos con el partido popular coincidíamos básicamente en casi todo

en su momento esta comisión de investigación y creíamos que había entendido su sentido detectar si existen responsabilidades administrativas ya que las penales habían quedado descartadas pero hete aquí que llegaron elecciones

acusaba a los socialistas de pactar con quienes tienen las manos manchadas de sangre el pp vasco o el pp del país vasco

con quién pues con estos mismos señores en función de los intereses políticos que tenga cada uno fíjese usted que aquellas conclusiones estaban acordadas entre el grupo nacionalista

popular y avalado por el portavoz del partido popular

lo que hasta entonces era coincidencia plena en las conclusiones de repente

a lo contrario y así llegamos a este pleno en vísperas a unas nuevas elecciones para que tres grupos de esta cámara avalen lo que la comisión de investigación no ha podido acreditar por eso voy a reiterar

y que no excusa ni esconde nada los hechos son los que son tanto la decisión judicial como el contexto en el que se produjeron los hechos qué decían aquellas conclusiones que nosotros presentamos conjuntamente con el partido popular que efectivamente habían existido prácticas colusorias por parte de las empresas

el número de lotes para favorecer la competencia que fue recurrido y ganado por las empresas adjudicatorias y hubo que volver al sistema anterior que no se había producido ningún caso de intoxicación alimentaria es decir que la seguridad alimentaria había estado absolutamente

y que evidentemente las empresas eran responsables de aquellas prácticas y por lo tanto se reconocía que el proyecto los sistemas de adjudicación eran claramente mejorables y que había que establecer el mayor número de cautelas y ser mucho más riguroso y más exigente a la hora de desarrollar los siguientes pliegos de condiciones eso es simplemente

que nosotros respetamos como lógicamente esperamos que respeten las críticas que les hagamos los demás y no estamos viendo los socialistas en esta votación conjunta

lo que vemos es que hay una decisión política tomada en que todo lo que sirva para un titular

y que esta por desgracia para ellos solo puede sumar para esto para bloquear o para paralizar pero desde luego para construir mayorías alternativas parece que no porque dudo mucho que los tres que hoy van a sumar para aprobar este dictamen tengan siquiera una idea compartida de cuál es el mejor modelo de comedores escolares y desde luego no tiene nada que ver lo que cada uno de ellos piensa sobre cuál tiene que ser el futuro modelo educativo

yo respeto una parte importante de las conclusiones rechazo otras como he dicho pero me parece que hoy se ha querido hacer aquí un poquito de teatrillo electoral eskerrik asko pastor jauna

señoras y señores en defensa del dictamen que ha aprobado la comisión de investigación en febrero de dos mil dieciocho el pleno de este parlamento aprobó la creación de una comisión de investigación de la gestión de los comedores escolares

y del nuestro propio los objetivos de esta comisión eran dos por un lado determinar las posibles responsabilidades políticas que pudiera haber y por otro lado determinar si hubo algún quebranto económico tanto para la administración como para las familias a día de hoy diez de octubre de dos mil diecinueve

consideramos que la comisión de investigación que impulsamos ha cumplido la misión que se le encomendó por un lado hubo un quebranto

mala gestión del servicio entre dos mil tres y dos mil quince gaur bozkatuko dugun txostenean

hemen daude emaitzak aquí están los resultados y los resultados de esta comisión de investigación concuerdan con lo que en dos mil dieciséis resolvió la autoridad vasca de la competencia y con lo que en dos mil diecisiete sentenció el tribunal superior de justicia del país vasco no son diferentes

son exactamente los mismos y este dictamen demuestra uno que las empresas adjudicatarias pactaron repartirse el mercado para alterar al alza los precios de los menús con el fin de obtener un beneficio ilícito y dos que como consecuencia de ello hubo

de entre setenta y ochenta millónes de euros concordante por cierto señor pastor con las cifras que en su día ya atisbó la autoridad vasca

y quiero decir aquí y responder al señor pastor porque esto ha sido una afirmación que él ha hecho repetidamente que las familias no han resultado perjudicadas por esta cuestión mire en dos mil tres las familias pagaban dos coma noventa y cinco euros el menú en dos mil doce pagaban ya cinco coma veinte

es cierto que entonces las cuotas se estabilizaron es verdad de dos mil doce a dos mil quince pero de dos mil doce a dos mil quince el gobierno ahorró un dieciséis por ciento

las familias empezaron dos mil tres pagando un sesenta por ciento del servicio y acabaron dos mil quince pagando un setenta y cinco por ciento del servicio eso no es ilegal

que el servicio tenía que ir a una autofinanciación pero esto significa que durante todo este espacio de tiempo han sido las familias las que han ido soportando

progresivamente el mayor coste del servicio y por lo tanto dentro del sobrecoste global a ellas es a quienes ha correspondido la mayor parte de este sobrecoste

no tiene conclusiones políticas pero sí es una comisión política para determinar cuáles fueron las responsabilidades

antes de la investigación de la autoridad vasca de la competencia y después de la investigación de la autoridad vasca de la competencia son conclusiones son responsabilidades no penales porque eso ya lo determinó la fiscalía

son responsabilidades políticas de quienes ostentaban la potestad de controlar el sistema

por establecer criterios de licitación cuestionables y esto lo dijo el tribunal superior de justicia del país vasco en una de sus sentencias donde decía

con requisitos de ejecución y la propia exdirectora de la autoridad vasca de la competencia afirmó que los pliegos de condiciones de la licitación si no contienen exigencias proporcionales

se pasa de la discrecionalidad a la arbitrariedad esto no lo dice la comisión de investigación esto lo decía el tribunal superior de justicia del país vasco

vasca de la competencia y hubo una pasividad en el control de la ejecución de los contratos y es cierto que los socialistas intentaron hacer algo pero es cierto también que los tribunales se lo tumbaron y por lo tanto usted ha dicho la palabra exacta intentaron

hasta dos mil doce como dice el dictamen no se hizo nada práctico para tratar de evitar esta

después quienes sí hicieron algo para evitar la práctica colusoria

defender el interés público porque cuando uno tiene una sentencia firme del tribunal superior de justicia del país vasco diciendo que ha habido unas empresas que han pactado el mercado para incrementar los precios

al mandato de este parlamento dado en marzo de dos mil dieciséis es ver hasta qué punto se ha producido ese sobrecoste y tratar de recuperarlo por todos los medios posibles

lo que no hizo el gabinete o el departamento de educación desde dos mil diecisiete hasta aquí que son quienes

por no haber acometido esa parte de su responsabilidad

interesante ha habido dos enmiendas que no se admitieron en la comisión que el grupo popular estimó oportuno no tenerlas en cuenta y que sin embargo

en las cuales hemos tenido acuerdos con el partido popular

una de ellas es la extensión de los programas piloto de gestión compartida de comedores entre centros y departamento de educación a otros centros que puedan ser interesados esa es la enmienda número treinta y nueve

recuperación de las cocinas escolares porque tengo que decir también aquí que el hecho de que cada vez nuestro sistema haya dependido más

que para la administración resulta entre un treinta y un treinta y cinco por ciento más caro a su vez ha incidido en un mayor control por parte de las empresas de cáterin del sistema por lo tanto nos parecen dos enmiendas interesantes de defender hoy aquí

todos los que van aprobar hoy el dictamen que se somete a votación y la mala noticia es que se les ha acabado el chollo

más jugo al tema de los comedores escolares no van a poder manosear este trámite no lo podrán alargar más llevan casi dos años

comisión y algunas de las escenas protagonizadas

son más propias de una comedia de enredo que de un parlamento serio por respeto y por educación no voy a citar todos los ejemplos que

los que hemos estado en la comisión los conocemos incluyendo filtraciones interesadas a la prensa en busca de un titular

previas a unas reuniones con supuestas deliberaciones secretas señor becerra y por último cambios

una enmienda a la totalidad con los grupos socialista y nacionalista y eso me dirigía a la señora de bengoechea pero veo que saliendo que excusar

un auténtico despropósito que perseguía solo perseguía

perseguía su desgaste no mejorar la contratación pública ni la gestión de los comedores escolares ni nada que tenga que ver con el servicio público o el servicio a los ciudadanos estamos ante el último acto

el último acto de una obra de teatro mal concebida

señor becerra señor barrio lastimosamente interpretada

se han desgastado a sí mismos señoras de eh bildu señores de elkarrekin podemos y señores y señoras del partido popular

erabakita zegoen arren y por qué digo que estaba todo decidido

pero no el señor becerra dice o dijo en su momento y es literal el sistema de gestión directa

por el departamento de educación no solo impide la autonomía organizativa de los centros no solo va en detrimento de la calidad de los menús no solo perjudica la economía local sino que además entre dos mil tres y dos mil quince provocó un quebranto patrimonial

fin de la cita más adelante dice el señor becerra que ese proceder contó con la pasividad del departamento de educación y que miles de familias vascas

por la negligencia del departamento de educación y que por supuesto había responsabilidades políticas juzgado y sentenciado se parece mucho

a grandes rasgos a las conclusiones del dictamen que vamos a votar hoy o que van a votar hoy igualito igualito diría yo

el problema es que estas palabras las pronunció el ocho de febrero de dos mil dieciocho está en las actas cuando no se había decidido ni votado todavía la creación de la comisión tenía usted dotes de adivino y no habíamos caído en la cuenta

y le han comprado un relato los unos por unas urgencias políticas y electorales y los otros por su histórica inadversión al partido que represento en todo caso

intereses espurios pero visto lo que decía becerra en

había que haber creado esta comisión de verdad hacernos perder el tiempo cuando las conclusiones ya estaban escritas llamar a diecinueve comparecientes para no hacer caso a ninguno perdón a una sí

en serio señor becerra nos podíamos haber ahorrado el trámite

ya lo ha comentado el señor pastor pero lo vivido en esta comisión ha sido una farsa ha sido una auténtica

y hoy tenemos la ocasión algunos de mirarnos a los ojos pero estoy seguro de que alguno que votará a favor de este dictamen no podrá hacerlo

pero este dictamen no es la verdad revelada y lo saben la verdad además no es votable la verdad es la verdad lo diga agamenón o su porquero como bien dijo en una ocasión la señora bengoechea en la propia comisión

no está la verdad no están los hechos probados qué pretensiosos son ustedes hablando de hechos probados hechos constatados

la verdad nada tiene que ver con una determinada correlación de fuerzas ni determinadas alianzas o mayorías parlamentarias por extrañas y antinaturales que nos puedan parecer y es lo que se concita de aquí una

pero no es la verdad y digo todo esto como introducción a lo que verdaderamente nos trae hoy aquí que no es otra cosa que el dictamen saliente de la no nata de la comisión de investigación porque no se investigó nada como se ha dicho por algún que otro portavoz

elaboró un informe que no concitaba demasiadas adhesiones

es el fruto de la aceptación de todas las enmiendas parciales presentadas por el señor

eh bildu y el partido popular estaban dispuestos a pagar un peaje del que en un principio rehúyan ellos sabrán por qué pero todos lo intuimos verdad allá cada uno con su conciencia el documento está trufado de verdades a medias más tramposas que la pura mentira verdades parciales con un único fin dañar al adversario político

y perversión de datos con frases elegidas a vuelapluma que lo único que pretenden es abatir al enemigo y que no aportan algo positivo a la sociedad

se debe hacer política señor becerra al servicio de este país y de sus ciudadanos se monta el espectáculo para aparentar que se estaban analizando las comparecencias y los documentos aportados

pero los hechos investigados ya quedaron acreditados en sede judicial con una conclusión clara

ninguno de los grupos no existe connivencia entre la administración y las empresas sancionadas repito no existe connivencia entre la administración y las empresas sancionadas al margen de eso es que ustedes

me pueden decir las consecuencias prácticas que van a tener sus conclusiones sería interesante la mayoría de los testimonios escuchados en comisión y también los informes echaban por tierra muchas de las conclusiones presentadas

sigue sin estar aquí no sé por qué la propia presidenta de la autoridad vasca de la competencia

que la cifra de ochenta millónes de euros que exhiben cada vez que tienen ocasión

no se basa en ningún estudio lo que sí se repitió una y otra vez en la comisión y se evidencia

primero que la responsabilidad de lo ocurrido recae en las empresas y no en la administración ha quedado demostrado que no hubo participación de funcionarios

y que tampoco existió connivencia como he dicho antes segundo que las adjudicaciones se han realizado siempre conforme a los principios de contratación pública y con los pertinentes informes técnicos la existencia de un pacto colusorio no fue deducida

tercero la administración ha sido en este caso la perjudicada pero ese daño económico no ha recaído en las familias

desde el año dos mil doce también se ha dicho por parte del señor pastor no se ha cambiado las cuotas de las familias pero ustedes erre que erre

ninguno de los comparecientes ninguno avaló esa tesis cuarto este gobierno con la consejera uriarte a la cabeza

para evitar casos como los enjuiciados y ser más garantista comenzó el cambio en dos mil trece al poco de asumir responsabilidades y el nuevo contrato se puso en marcha en dos mil quince un nuevo modelo de contratación

tiene el aval de la autoridad vasca de la competencia más a más el pasado año se realizaron quinientos ocho auditorías sin aviso previo para analizar el grado de cumplimiento de las condiciones del contrato la calidad de los menús y las condiciones sanitarias la calidad quedó acreditada por cierto entre los cambios impulsados por citar tan solo uno está el incremento de lotes de diez a dieciocho

de menor tamaño pueden y podrán acceder todas estas cuestiones han sido obviadas o escondidas orilladas en el informe

pero fueron explicadas con profusión por los comparecientes que se explayaron también

y de máxima exigencia que garantizara la igualdad y la calidad alimentaria y la seguridad alimentaria

esos testimonios quedan relegados por qué pues

porque la comisión no se creó para eso se creó para dar nombres

en el escaparate público usted lo acaba de hacer señor becerra anjeles iztueta y tontxu campos por eusko alkartasuna isabel celaá del partido socialista

el informe sitúa a todos ellos la responsabilidad política de no haber detectado la concertación de empresas y de no haber diseñado mecanismos de control más rigurosos

año al que se remonta la investigación de la comisión

pero no pueden dar esos que compran ese relato no pueden dar pábulo a tal responsabilidad lo dan

todos sabemos que estamos en un juego de mayorías y de política de salón

las verdades me parece una indecencia manchar el nombre de todos ellos si bien como euzko abertzaleak tengo que

de la labor de la consejera uriarte y su equipo la presidenta de la comisión

poco ha importado que los hechos investigados fueran de años anteriores a la gestión del actual equipo

introdujese una serie de mejoras para aumentar la competencia y ganar en transparencia poco ha importado acusar a un gobierno de actuaciones en las que no ha participado no participó señor becerra todo eso se ha obviado y se ha pretendido blanquear situando las responsabilidades

en todos sin excepción insistimos al poco de llegar al gobierno y en cuanto pudo introdujo cambios

como han pretendido trasladar los grupos de la oposición y en especial

una actuación muy determinada para poder aumentar la competencia entre las empresas y hacerlo y esto es importante

no son ahora válidos para los fines que persiguen y por eso personas completamente ajenas a la comisión y sin los conocimientos

otro relato que casualidad o no es el mismo que el de eh bildu no se puede hacer no se puede hacer política desde el revanchismo y la venganza señores del partido popular en esa estrategia de ataque al gobierno vasco eh bildu y pp

y se retroalimentan son enemigos políticos que no dudan en pactar cuando les interesa se pelean se vetan ante la opinión pública

pero no dudan en ir de la mano cuando les interesa puro

larraitz ugarte presidente andrearen jokaeran nada es casual en el comportamiento de la presidenta

en puertas de la campaña electoral para las generales convocó la comisión el seis de mayo antes del inicio de la segunda campaña electoral

vio que existía riesgo de que los trabajos de ese foro concluyeran sin

y convocó de nuevo la comisión justo en la última semana del anterior periodo de sesiones sabiendo que al menos hasta el mes de octubre no podría ir a pleno hoy

no nos engañemos todo responde a una estrategia medida de tiempos cuando ha visto a un pp

ha aprovechado la oportunidad para atraerle a sus posiciones y asegurarse la mayoría suficiente voy concluyendo presidenta para euzko abertzaleak está claro que estamos ante un juicio político la única motivación que han tenido los grupos de la oposición no ha sido la de pensar en el interés de las familias ni en la calidad del servicio

era desacreditar al actual gobierno y para ello no han dudado en desnaturalizar el verdadero sentido de una comisión de investigación el desnaturalizar las instituciones el parlamento convirtiéndolo en un instrumento de oportunismo político poco les importaba la realidad

de lo que allí se dijo nada de lo que allí se dijo fue recogido en el informe de conclusiones

sus conclusiones estaban ya hechas previamente para desgastar

muchas gracias presidenta mire señor latxaga es que

por lo menos ha reconocido algunas cuestiones de las que han sucedido en relación con el quebranto económico con la concertación de empresas y se ha podido referir y ha hecho un análisis crítico también de la actuación de la administración usted

calificar el trabajo de una comisión de investigación

y hasta el último momento y hoy mismo y al parlamentarismo usted le ha llamado

politiquilla de salón mire trabajamos sobre textos sobre documentos sobre acuerdos políticos

o entendemos nuevas cuestiones o alguien nos aporta cosas que de verdad entendemos y que de verdad sirven para mejorar los sistemas señor latxaga es decir entienda usted que no se puede venir aquí a hacer una retahíla de descalificaciones

yo creo que no se ha leído el dictamen yo creo que tampoco ha analizado en relación

los anexos que vienen en el dictamen que prueban exactamente el quebranto económico que lo prueban desde un punto de vista que nosotros hemos comprendido o asumido es decir eso no se ha dicho que no nadie

anexos y esos estudios que se hacen en relación con lo que forma parte de lo que la autoridad vasca de la competencia dijo es decir que no nos hemos inventado los demás y desde luego no se los ha inventado el señor becerra que yo creo que ha hecho un gran trabajo en esta comisión de investigación o sea que en ese sentido yo creo que ya al final hablaba el señor latxaga de

ha puesto sobre la mesa toda una retahíla de descalificaciones sin entrar en materia en la materia que hemos entrado los demás yo

oportunismo político no es una oportunidad para la administración es una oportunidad para la administración porque yo le he dicho al principio que hemos hecho un dictamen ha sido con lo que he

sólido sin acritud y constructivo y eso es lo que quiero que se mantenga como

a llegar a estas conclusiones a estas recomendaciones a lo que ha sido

el quebranto económico está perfectamente explicado señor pastor en el dictamen y en sus anexos yo creo que está

explicación de cálculo matemática incluso en relación con lo que ha sido el quebranto económico a partir de los datos

para la administración y para las familias lo ha explicado perfectamente antes el señor becerra y es precisamente esa autoridad vasca de la competencia la que fundamenta el cálculo de ese quebranto

que la administración es decir pero si ha sido el tribunal superior de justicia del país vasco el tribunal superior de justicia del país vasco quien ha dicho que en la administración ha habido falta de reacción falta de indagación

por lo que haya que condenar pero esa ha sido la actitud de la administración en relación con ese tema ya sé que duele pero

fino en relación con lo que ha sido un trabajo parlamentario que podrá gustar o no

en general y lo ha habido para las familias desde luego que hubiesen pagado menos si los precios hubiesen sido menores es decir que eso está claro

los dos del dictamen y escuchen las explicaciones que ha dado el señor

trabajamos en la comisión escuchamos los testimonios vimos los documentos

califican todos ustedes no el señor latxaga fundamentalmente califica como una

una oportunidad una oportunidad de analizar datos

que forma parte de lo que todos vemos cuando se presenta un proyecto de ley o una proposición no de ley en este caso una comisión de investigación donde algún grupo parlamentario aporta cuestiones que son relevantes fruto de un trabajo importante y relevante y que nosotros saludamos y que hacemos nuestro

eso es lo que hemos hecho señor pastor hicimos ese análisis

datos las nuevas referencias de la comisión de investigación y las enmiendas

de elkarrekin podemos y estamos orgullosos de alcanzar acuerdos claro que sí eso es lo que pasó es

convencidos de que a partir de lo que la autoridad vasca de la competencia a partir de lo que los tribunales habían dicho en relación con lo que había sucedido a partir de testimonios también de particulares que han sido relevantes

por dar la voz de alarma en relación con lo que había sucedido pues bueno nos pusimos a trabajar y

nuestro trabajo y eso ha sido de lo que estamos orgullosos y vuelvo a decir hay unas conclusiones es decir que usted ha maximizado están ahí forman parte de los acuerdos

en relación con los hechos constatados claro que son hechos constatados pero si están perfectamente explicados

son no no son hechos constatados hay que leerse el dictamen de la comisión de investigación hay que leerse el dictamen señor latxaga de los antecedentes en primer lugar porque enmarcan

hay que ver que en la parte fundamental una de las partes fundamentales del dictamen son las recomendaciones las recomendaciones en todas esas cuestiones en relación con

con todo lo que antes hemos dicho en relación con una capacidad de actuación de la administración y con las conclusiones claro que ha habido responsabilidades políticas alguien hablaba de un juicio político desde luego lo que no es es un juicio penal desde luego esto no es un juicio penal

hablamos políticamente calificamos políticamente una situación

ha habido muchas comisiones de investigación en esta cámara yo sé que las comisiones de investigación son momentos abruptos en la vida parlamentaria lo son lo son porque algunos

políticamente actuaciones de anteriores dirigentes gubernamentales

hay que asumirlos señor latxaga y desde luego nosotros

llegar a un acuerdo en relación con unas enmiendas y de actuar en puro sentido parlamentario es decir señor latxaga esto no es un teatro esto no es una farsa esto no es politiquilla de salón

ninguna necesidad de montar esta comisión de investigación porque lo sustancial

tanto la autoridad vasca de la competencia como los tribunales y eso es lo que ha provocado de modelo de hecho ya se intentó en la anterior legislatura a instancias de ustedes señores del pp también montar una comisión de investigación sobre el tema de comedores escolares bildu no aceptó

cosa que es una conclusión que también aparece pero que ya estaba

por la administración educativa en aquel momento y yo señor becerra no he visto en ningún sitio ese informe de los ochenta millónes de la autoridad vasca de la competencia en ningún sitio y yo he oído a los comparecientes al igual que usted ellos han hablado de un quebranto económico

el tribunal superior de justicia del país vasco y lo reduce por cierto sustancialmente ese quebranto económico y desde luego vamos a ver no es cierto

y dónde está ese reconocimiento en las conclusiones de la comisión de investigación

solo dice que no se hizo nada durante todo el proceso

cosa que no es cierta entonces si ustedes dicen que han hecho una cosa absolutamente rigurosa

pero no solo porque lo dijera y lo detallara

pero es que la propia autoridad vasca de la competencia en sus actas establece aquel momento en el dos mil diez en el que se puso en marcha un cambio de procedimiento de adjudicación

y también dice que fue recurrido y ganado por las empresas adjudicatarias

juego limpio insisto usted me hará todos los cálculos que quieran sus anexos

ocho o diez años y comprobará lo que yo digo

salvo el ipc por lo tanto no parece que sea tan así como usted defiende aquí ardorosamente y después vuelvo a reiterar el tema de la gestión directa de los centros para los comedores escolares que a nosotros también nos parece interesante no es ninguna aportación

asumido al menos a título de experiencia piloto por parte de la administración y es verdad yo tengo que reconocer que bildu ha sido más prudente

las reflexiones probablemente porque de los cuatro consejeros que se investigaban uno no estaba por cierto por esa parte se dejó fuera ese asunto y se puso en marcha con el señor después continuó con el señor

y finalmente por la señora celaá y salvo la señora celaá todos ellos militantes de eusko alkartasuna que están integrados ahora mismo en euskal herria bildu probablemente eso haya motivado que hayan sido algo más prudentes a la hora de plantear

lo que no le puedo comprar bajo ningún concepto es que ustedes han tenido una actuación seria rigurosa y científica en esta comisión no es verdad porque durante año y pico su representante en la comisión de investigación

todas y cada una de las comparecencias que se han ido produciendo llegó a un acuerdo con este partido

sobre determinadas conclusiones y coincidíamos en el análisis y en las conclusiones

de la noche a la mañana resulta que ustedes hacen una profundísima reflexión reanalizan todo lo que había pasado durante año y medio y concluyen que se habían equivocado hasta entonces el año y medio anterior

y les habíamos engañado y entonces cambian de blanco al negro y deciden que lo que tenían

reflexionado y firmado y firmado no solo por uno sino por dos representantes del partido popular ya no vale para nada y entonces

porque quedaba mal ante la opinión pública que el partido popular que fue

por boca del señor oyarzábal se había cansado de hablar del quebranto de las familias vascas etcétera etcétera de que era un precio muy caro de que éramos unos

eso quedaba muy feo en vísperas de un periodo electoral y entonces había que cambiar el chip

de defender lo que no defendía en aquel momento pero esa es la realidad de los hechos

es incomprensible ilógico indefendible lo que han hecho ustedes con esta comisión el lunes firman y el martes retiran la firma y firman lo contrario

y qué me quiere decir que el grupo parlamentario popular se reunió durante toda esa noche previa para analizar discernir y concluir

es un insulto a la inteligencia lo que usted ha querido hacer aquí eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

vamos a ver señor latxaga usted me atribuye a mí una capacidad de ser flautista de hamelín

porque si yo opinaba una cosa en dos mil dieciocho imagino que sería porque había conseguido convencer a la autoridad vasca de la competencia en dos mil dieciséis y al tribunal superior de justicia del país vasco en dos mil diecisiete

efectivamente yo hablé de ochenta y cuatro millónes no hablé solo de ochenta y cuatro millónes hasta de ciento treinta porque no tenía los datos del gobierno fue necesario

que no era tanto el dinero que eran solo entre setenta y ochenta millónes

me atribuye a mí personalmente una capacidad

al gobierno del lehendakari ni tengo la capacidad ni tengo la intención ni a este gobierno ni tampoco al del señor ibarretxe ni al del señor lópez que también

lo que sí tengo intención es mientras esté en este parlamento de poner de relevancia aquellos casos de mala gestión que también los tiene este gobierno como los tienen todos los gobiernos con qué consecuencias prácticas pues no lo sé a mí me gustaría que algo cambiase desde luego porque si hemos a refrendar una autoridad independiente como la autoridad vasca de la competencia un tribunal superior de justicia y una comisión de investigación parlamentaria lo mismo exactamente lo mismo

pues lo suyo es que algo cambie pero tampoco tengo ni mayor intención

una comisión de investigación no está al servicio del gobierno está al servicio del país le guste a usted o no le guste

el gobierno tuvo la oportunidad tuvo la opción de hacer lo que ha hecho esta comisión de investigación porque coincido con el señor pastor que posiblemente no sería necesaria

este parlamento por mayoría aprobó una moción en la que instaba en el punto número dos al gobierno vasco a que estudie si se ha producido un daño patrimonial

y le instaba también a que los servicios jurídicos inicien cuantas acciones legales sean necesarias para resarcir a las arcas públicas de los daños y perjuicios causados dónde están esas acciones

también instaba al gobierno vasco a intensificar los trabajos con los diferentes agentes implicados con el objetivo último de adecuar el modelo de gestión

seguimos con el mismo modelo de gestión tres años y medio después

su problema en este caso el de su grupo es que

al servicio del gobierno y no les ha pasado así ustedes presentaron una enmienda a la totalidad

cuando el plazo terminaba el dos de mayo y nuestro grupo presentó sus enmiendas el veintitrés de abril

y aprobadas o no por todos los miembros del grupo tengo que agradecer aquí expresamente al grupo popular que a la vista de nuestras enmiendas cambiaran su intención de voto

eso es lo sensato ver qué propone cada grupo para ver si podemos construir algo más allá

verdades parciales que a veces se constituyen para tapar y para pasar de puntillas sobre los casos de mala gestión pero esta vez

no es por responsabilidad de este humilde parlamentario sino por la incapacidad que han tenido ustedes de dar respuesta a un asunto que es un escándalo mayúsculo

y si no lo han hecho ahora se encuentra como se encuentran y no es responsabilidad del resto de los grupos gracias eskerrik asko becerra jauna

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea después de oír las últimas intervenciones

un juicio político el propio carmelo barrio así lo ha confesado

patente aquí con todas las intervenciones que han tenido los miembros de elkarrekin podemos y del partido popular y que la única motivación que han tenido los grupos de la oposición

ni la libre competencia señor barrio es una estrategia pura y dura de desgaste al gobierno

y ustedes cuando necesitan desgastar al gobierno se buscan y se encuentran

se lleven a matar practican una hipocresía política notable

pero comparten el mismo objetivo minar la credibilidad de un gobierno al que la ciudadanía vasca respalda de forma mayoritaria y no lo consiguen en las urnas y lo buscan a través de estrategias de ataque al ejecutivo y al pnv lo vemos todos los días en este parlamento

me hace muchísima gracia que sea usted precisamente usted el que me tache de que no he andado fino

en mi intervención de que no he entrado a las conclusiones de que no he leído el informe precisamente usted me tiene que decir a mí eso

hemos estado año y medio asistiendo a todas las comparecencias y solicitando toda la documentación sabe lo que ha hecho usted señor barrio algo así como tendente a cero usted ha aparecido por allí en el último minuto

tiene su aquel la señora

es la que se tragó todas las comparecencias y estudió toda la documentación y la que de alguna forma hizo un diagnóstico un diagnóstico de acuerdo a lo que estaba viendo y a lo que estaba

mire por educación y por respeto a su compañera señora bengoechea me voy a

de esta cámara usted sabe todos sabemos lo que ha pasado en esta comisión de investigación y cuál fue la caída del caballo del partido popular todos lo sabemos no me hable de trabajo concienzudo

por favor un poquito más de respeto a esta cámara mendacidad

exhibiendo hoy aquí por favor como he dicho

y si alguien tiene dudas que consulte las actas y los vídeos que están a disposición de todos los que

por no decir nada usted señor barrio

y ha tenido que tragarse un sapo punto admítalo pero no nos venga aquí contando haciendo confabulaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad y acusándonos a nosotros de no entrar en el debate pero si el debate estaba trucado de antemano si

es testigo de que las propuestas hemos hecho propuestas cosa que el partido popular y usted personalmente no ha hecho ninguna o sea que hemos tenido cierta correspondencia

un poquito de respeto a esta cámara buen servicio un soldado fiel pero hasta ahí por parte de euskal herria bildu

que efectivamente el más prudente en cuanto a las responsabilidades políticas ha sido euskal herria bildu y los miembros de euskal herria bildu en esa comisión

sea así pero es tal la inquina que le tienen al partido nacionalista vasco

sobre los asientos de los grupos que apoyan al gobierno no tienen empacho ni escrúpulos en manchar el nombre de dos consejeros que ahora militan en su formación política la trayectoria y los testimonios del señor campos y la señora iztueta fueron

pero da igual les endosa una responsabilidad política que solo ustedes ven

sin piedad por último señor becerra enhorabuena porque se ha convertido como he dicho antes en el actor protagonista

se le ve muy a gusto en el papel de azote del gobierno fuera de su txoko

y apocalíptico se está sí

isiltasuna necesitaban todas las partes

le compraron su relato que aparentemente da el pego aunque su relato

está falto de sinceridad y lleno de mendacidad por mucho que una mayoría parlamentaria votase que ahora es de noche la verdad

pasa lo mismo con este dictamen lo mismo exactamente lo mismo y me parece muy lícito que quiera labrarse un nombre pero no a costa de cualquier costa

de una caza de brujas inquisitorial eskerrik asko latxaga jauna

esto no es un juicio y les digo también que yo en esta cámara

no quisiera porque seguramente iba a haber demasiadas trampas esta comisión de investigación ha sido una oportunidad

está para vigilar el trabajo del gobierno tan sencillo es que no es un juicio es que no es nada malo es que debería ser lo habitual que si algo no se hace bien se entre a una comisión de investigación sin ningún complejo sin ningún complejo señor latxaga

ha sido positiva euskal herria bildu no ha mirado para otro lado podía haberlo hecho pero no hemos estado encima hemos sido responsables porque euskal herria bildu en este caso

es más estamos contentos y contentas estamos contentas porque era necesaria

se queda encima de la mesa lo que ha sido cuatro conclusiones muy concretas esto es una garantía de transparencia es que nos corresponde hacerlo así además y las conclusiones son claras un ejemplo de funcionamiento de una comisión de investigación han pasado un montón de personas afectadas y viéndolo además como una oportunidad las conclusiones absolutamente claras

queda acreditado el sobrecoste eso es así y sobre todo recae

queda acreditada la inacción política y eso es lo más grave de todo efectivamente la administración detrás de una denuncia no había movido

es así pero no pasa nada para eso esta comisión y para

y la última queda acreditada también la necesidad de un cambio de modelo de comedores tan sencillo

ya está dando pasos en eso confiamos en que dé pasos yo creo que nos deberíamos quedar con eso es más nos quedamos con eso con la falta de control con la inacción con mirar hacia otro lado pero hoy se cierra una puerta

tan sencillo porque hay una oportunidad de recoger esas recomendaciones y de ponerlas en marcha otro modelo no solamente es posible sino que es que ya es necesario

lo está pidiendo también las personas afectadas también las familias también las trabajadoras

y ya euskal herria bildu tiene una propuesta ya la hemos comentado más veces y tendremos oportunidad próximamente además de debatir

unas recomendaciones para cambiar las cosas para que la igualdad de oportunidades en los pliegos de condiciones en la contratación pública sean para todos y todas en las mismas condiciones tan sencillo

tendrá que dar autonomía a las comunidades escolares porque tiene que ser así tiene que mejorar tiene que ser una oportunidad también para el territorio para las personas para todos los que usan por cierto días atrás se firmaba aquí pactos pacto por la

otro pacto con iniciativas para alimentación saludable cojamos la mano los comedores pueden ser un pacto pueden ser un pacto y una oportunidad acabo

esta es una oportunidad de regeneración democrática es algo tan sencillo este parlamento tiene la obligación de vigilar al gobierno aunque a muchas personas de aquí de esta cámara no les guste no es más tenemos oportunidades hoy encima de la mesa para que estas comisiones de investigación sirvan de algo tenemos la ope de osakidetza

la obligación de dar cuentas como políticos que somos de cómo la administración está trabajando y está funcionando pedimos responsabilidad política repito euskal herria bildu ha hecho política en mayúsculas da igual quién estaba creemos que tenemos que ser responsables con quienes han estado y con quienes estamos en esa estamos euskal herria bildu tiende la mano al gobierno para seguir trabajando porque no tenemos otro remedio que hacer un pacto

iraupen luzeko langabe batzuei egunkari batzuetan eginiko elkarrizketak ekarri genituen atril honetara se han olvidado de nosotros decía una de las personas nos han dejado solos y no voy a volver a trabajar

la menor tasa de desempleo hace más difícil reducir la cifra de los que llevan más tiempo buscando empleo porque en su mayoría son dificultades estructurales las que presentan y muchas son las dificultades que presentan para engancharse a alguna actividad el último informe

a la cabeza de la cronificación del desempleo en el estado de los datos de la última encuesta de población activa

en dos comunidades muy diferentes en cuanto a su estructura económica

la diferencia es que nuestra tasa de desempleo está por debajo del diez por ciento y

y también estamos a la cabeza a nivel europeo muy lejos de la media europea del desempleo de larga duración que se sitúa en el veintidós por ciento

lejos muy lejos de las tasas de desempleo de larga duración que presentan los países con una capacidad de generación de riqueza como la nuestra

estamos muy lejos de la situación que teníamos en dos mil siete por ejemplo antes de que estallara la crisis económica

de larga duración se situaba entonces en un dieciséis por ciento y ahora está en torno al cincuenta

erdibideko ebaluazioan ere euskal herria bildu ha insistido a lo largo de esta legislatura en la necesidad de dar una respuesta efectiva a estas personas

a esas personas que van perdiendo capacidades y que tienen cada vez más dificultades para escapar del desempleo tres fueron los intentos

a un acuerdo para desarrollar una estrategia definida y diseñada para dar respuesta

a las personas desempleadas de larga duración y en efecto en junio del dos mil dieciocho conseguimos un acuerdo un buen acuerdo alcanzado por unanimidad

de que el gobierno dejara esa estrategia de meter a todas las personas con especiales dificultades para la inserción en un mismo saco y se centrara

una estrategia específica diferenciada especializada y prioritaria para este colectivo

es un elemento muy diferenciador de nuestro desempleo acordamos complementar

para dar respuesta a las personas paradas de larga duración contemplando entre otras iniciativas encaminadas a que se garantizara una atención personalizada a estas personas que les ofrezca medidas concretas de formación orientación e intermediación

que contemplara incentivos masivos para la contratación que contemplara también la incorporación de cláusulas para la contratación de parados de larga duración en la contratación pública

y certificara la experiencia laboral y que estableciera las vías para vivir dignamente

ante situaciones excepcionales decíamos entonces medidas excepcionales como se hace en otros muchos ámbitos medidas de choque y recursos excepcionales conscientes

social y también económico que el desempleo de larga duración tiene hemos seguido muy de cerca las actuaciones de este gobierno en esta materia y el cumplimiento de lo acordado

concluir que estamos ante una versión actualizada de las actuaciones que ya se venían desarrollando en lo referente al desempleo de larga duración consideramos y constatamos que el acuerdo alcanzado por unanimidad en este parlamento no ha dirigido

me remito al plan operativo dos mil diecinueve donde deberíamos haber encontrado los primeros indicios de voluntad de cumplir este acuerdo no hemos encontrado nada es más en el plan operativo del dos mil dieciocho se contemplaba en su ámbito operativo quinto de inserción laboral de colectivos desfavorecidos

el facilitar el acceso al empleo de quinientos cincuenta personas desempleadas de larga duración a través de actuaciones integrales quinientos cincuenta personas

significativo sin embargo en el dos mil diecinueve ese mismo objetivo específico deja de ser específico para las personas desempleadas de larga duración para serlo para los colectivos con especiales dificultades de inserción

de esta actuación diferenciada especializada y priorizada para estas personas y también

y hemos preguntado sobre las medidas específicas que deberían servir como elemento

y se nos habla del impulso de planes comarcales y locales para la contratación de personas menores de treinta años en los municipios con mayores porcentajes de desempleo juvenil

se nos habla también de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo dirigido especialmente a esas zonas y municipios

con un presupuesto de diez millónes que seguramente todas ellas serán actuaciones que tendrán incidencia

en las personas paradas de larga duración pero que no son una actuación ni específica ni orientada específicamente a este colectivo

que sí está destinada a personas desempleadas de larga duración

una convocatoria que se puso en marcha en septiembre de dos mil diecinueve

euros para aproximadamente se dice cien personas cien personas cuando estamos hablando de cincuenta y seis mil que están

cuando por ejemplo en el desempleo juvenil estamos hablando de seis coma cinco millónes

del empleo en zonas desfavorecidas

la única actuación específica con un presupuesto reducido y con un alcance

al que pretende dar respuesta y hay que añadir las características de esta convocatoria yo creo que son muy a tener en cuenta

sortzen diren aukera horiek lan baldintza duinetan ematea eta hemen planteatzen ari dena da contratos de novecientos euros con cotización mínima que puede ser de seis meses

personas que están en los últimos años de su vida laboral y con las consecuencias que ello tiene y ojo con los mensajes que envía este gobierno al mercado laboral novecientos euros

relativa de bajos ingresos en esta situación me parece que es un tema bastante cuestionable sobre la atención individualizada yo creo que es evidente que no hay nada todas sabemos

por cierto lanbide y su proceso de modernización que es otro debate que nunca llega

de un planteamiento específico con sara de la rica y la universidad pues tampoco hay nada nuevo ez dago paradigma aldaketarik gauzak egin bai

eta horregatik gaur gaia eztabaidatzearen garrantzia consideramos necesario un impulso consideramos necesario salir al rescate de estas personas

con una coordinación sistemática con las agencias de desarrollo local

prospectivo público para proporcionar respuestas estructurales a este tipo de situaciones que garantice

y que impulse la inclusión de criterios de contratación de personas desempleadas de larga duración en la contratación pública y que contemple una evaluación profunda de la efectividad de las medidas y es a eso a lo que ustedes van a decir que no

bai egun on bueno nosotros vamos a reconocer que la señora

de eh bildu es bastante reiterativa es que no te ubicaba ahora barkatu es bastante reiterativa y no sé si con este asunto

le van a recriminar que sea reiterativa con un tema en el que en la última ocasión que lo trajo a la cámara llegamos a un acuerdo nosotros

sí le vamos a recriminar que sea usted reiterativa pero en un sentido positivo

nos parece que cuando abordamos un problema y meses después el problema sigue ahí independientemente

o con un acuerdo que nosotros entonces consideramos positivos y nosotros hoy vamos a seguir considerando positivo

sigue siendo oportuno ser reiterativo y traerlo a la cámara por lo tanto nosotros saludamos la iniciativa hemos llegado a un acuerdo fácilmente con el grupo eh bildu

compartíamos objetivos y sobre todo porque compartíamos contenido porque creo que los objetivos es fácil

en el anterior debate quién no va a compartir que el problemas de los empleados de larga duración con miles de personas en torno a unas

desempleadas y desempleados de larga duración combatir y reducir de manera notable esto no es un objetivo que compartamos bien ahí lógicamente va a estar de acuerdo

debate y aquel acuerdo y meses después lo ha dicho también

la señora kortajarena nos encontramos en una situación muy similar es verdad

se ha dicho también se ha reducido pero se ha reducido de una manera muy pequeña y relacionada con la reducción del desempleo producto también del ciclo económico

pero es que en euskadi estamos hablando de que a día de hoy el sesenta por ciento de los desempleados son desempleados de larga duración y creo que sigue siendo la peor cifra en el conjunto del estado y por lo tanto tenemos un problema un problema grave y que los expertos algunos han sido mencionados también en la anterior intervención han definido como problema estructural esto ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones y por lo tanto si tenemos un problema estructural un problema grave que afecta a miles de personas y que les afecta de una manera

que tenemos que volver a abordarlo y tenemos que ver qué es lo que falla y qué es lo que ha fallado

el contenido nosotros pensamos que a pesar del anterior acuerdo no hay una política específica destinado a los parados y las paradas de larga duración a nosotros nos da igual llamarlo plan de choque como se ha llamado generalmente en la transacción

tienen un tiempo corto limitado y siendo realistas pensamos que ni con el mejor plan de choque

plazo de tiempo es lo que tiene el mercado capitalista es muy complicado acabar con el desempleo y con el desempleo de larga duración

nos vale que sea plan de choque pero lo importante sobre todo es que sea específico en el anterior acuerdo

especificidad concreta con respecto a los desempleados y las desempleadas de larga duración

resultados y por lo tanto nos parece interesante que se vuelva a plantear y por eso nosotros nos hemos sumado en esa transacción que se vuelva a plantear una política concreta especifica para dirigirnos a las y los desempleados de larga duración conocemos las características incluso

orientación intermediación es decir atención individualizada pero lo cierto es que comprobamos que eso a día de hoy por diferentes razones no se hace

o la columna vertebral de lo que se está haciendo se caracteriza fundamentalmente por las ayudas a la contratación es un viejo sistema

sin demasiados requisitos lo cual además repercute en otra de las características en la que supuestamente estamos de acuerdo los diferentes grupos cuando décimos que debemos abordar esta cuestión que es que los empleos sean de calidad que sean

hemos querido introducir como en anteriores ocasiones para nosotros es importante la dimensión o el papel que puede jugar la administración pública

que de esta puedan derivar nosotros sabemos que en esto no vamos a compartir con otros grupos pero nosotros pensamos que la administración pública y la utilización de la ampliación de los servicios públicos también como herramienta de creación de empleo puede ser

disminuir las tasas de desempleo y para abordar la cuestión de los desempleados y las desempleadas de larga duración creemos que ahí hay un potencial

para ampliar y generar nuevos servicios públicos que den mejor servicio a la ciudadanía y que además estamos convencidos pueden ser sostenibles económicamente y luego incluimos una cuestión en la que también hicimos hincapié en el anterior debate y que no voy a decir que no se haga nada pero que creemos que hay mucho margen de mejora que es la cuestión de la certificación de conocimientos de las personas desempleadas de larga duración en este caso especialmente

caras curiosas usted podrá salir luego aquí a defender que con esto ya se está haciendo todo lo que se puede hacer me parece muy legítimo yo

que no digo que no se haga nada pero que creemos que hay margen mucho más con personas en este caso que tienen larga experiencia laboral pero que desgraciadamente no pueden tener determinadas titulaciones que en estos momentos son

recolocación en puestos de trabajo y en último lugar también hemos incluido en la transacción dos cuestiones que a nosotros nos parece que no se pueden desligar de las políticas dirigidas a las y los desempleados de larga duración que tienen que ver

a nosotros nos parece que cuando hablamos en el parlamento vasco de las políticas dirigidas

de que estas personas en su día a día cotidiano necesitan de estas prestaciones que además son un derecho y también

incluirlas y hablar de ello sobre todo por una cuestión porque estas prestaciones

en la última década por lo tanto volvemos a platear somos insistentes en esto la vuelta al smi como indicador para la subida de la rgi

de manera importante a muchas personas desempleadas de larga duración nos parece que se tiene que hablar de esto también cuando hablamos de estas personas

de instar a aquellas instituciones que tienen las competencias para mejorar las coberturas por desempleo las prestaciones que fueron recortadas a partir de los ciento ochenta y uno días de desempleo y que por lo tanto afectan de manera muy directa a las personas desempleadas de larga duración y sobre todo los subsidios

brutalmente recortados que estaban en

pero que siguen recortadas y por lo tanto nos parece que no está de más incluirla aquí nosotros pensamos que la transacción es una transacción

del gobierno porque pensamos que no se está haciendo unas políticas especializadas dirigidas a un colectivo tan amplio y tan delicado

desempleadas de larga duración pensamos que la clave de esas políticas

una política para programar para realizar programas de recolocación adecuados las ayudas a la contratación que se hacen en este momento

con políticas para una correcta recolocación de las personas desempleadas de larga duración por lo tanto aunque nosotros pensamos que aquel fue un buen acuerdo pensamos que hay que cambiar determinadas políticas y por lo tanto nos parece bien que en este caso eh bildu traiga esta iniciativa la hemos transaccionado
y creemos que al menos una parte de ella va a salir adelante y por lo tanto nos alegramos eskerrik asko hernández jauna

egun on guztioi vamos a redebatir una

que ahora reconvertimos en el título bajo la denominación de puesta en marcha de un nuevo plan de choque permanente para atender de forma adecuada a las personas con paro de larga duración una reconvertida

de que este pleno acordara por unanimidad de la cámara la incorporación a los planes anuales de empleo que han de desarrollar el plan estratégico dos mil diecisiete dos mil veinte sobre el que también consensuamos medidas de choque para atender correctamente a las personas desempleadas de larga duración

esa es la fecha de caducidad del acuerdo para eh bildu de un acuerdo unánime que instaba a la incorporación de medidas específicas para atender a este colectivo en el desarrollo de un plan que tienen como vigencia el dos mil veinte seis meses señora kortajarena un acuerdo que se tildó por la proponente

muy contenta la verdad es que visto con la perspectiva del tiempo desde hoy hacia atrás sinceramente a mí me parece una tomadura de pelo más si tenemos en cuenta el detalle de que después de declarar unilateralmente la caducidad de dicho acuerdo

hasta decidir casualmente airearlo en esta sesión lo registra en febrero lo trae en octubre porque

y se nota lo trae cuando le preocupan y a uno una tiene que vencer la tentación cuando se enfrenta a este tipo de calculadas estrategias

lo que la lógica común de la calle se lo diría sin ningún tipo de problema pero esto es cortesía parlamentaria entonces una vez superada

le voy a recordar muy brevemente pero muy brevemente desde esta

se han producido en esta legislatura y si alguien tiene curiosidad por profundizar en lo que fueron los debates los argumentos y los acuerdos alcanzados aquellos que fueron tildados por acuerdos

y potentes de cara al futuro que así consta en el diario de sesiones pues que se relea con cierto interés el acta de los plenos del día diez de mayo y siete de junio del dos mil dieciocho y yo así no les canso hoy reiterándoselo hablaba yo de hitos primer hito fue la aprobación del plan estratégico del empleo dos mil diecisiete dos mil veinte un plan

en respuesta a la detección de un riesgo que es la temporalidad y la parcialidad no deseada y a la necesidad de generación de oportunidades reales para aquellas personas que presentan una menor

una estrategia que mejoramos con un acuerdo unánime también de esta cámara planes anuales que desarrollen hasta el dos mil veinte esta estrategia basados en cinco pilares

la potenciación de los planes de empleo como herramienta de inserción los incentivos a la contratación y la acreditación de conocimientos por la experiencia laboral tendría tentación de leerles el acuerdo y la verdad es que me lo he bajado pero después de las intervenciones creo que no

los socialistas pensábamos entonces y pensamos ahora que no errábamos cuando se aprobaron estos instrumentos cuando aprobamos esta dirección cuando aprobamos estas líneas

a otros que han intervenido que sin tiempo de implementación ni de evaluación porque su preocupación por preguntar al gobierno vino en el mes de septiembre dan por finiquitado el acuerdo alcanzado pues permítame que no le acompañe en este viaje para los socialistas el acuerdo que alcanzamos entonces con ustedes

popular es un acuerdo vigente es un acuerdo que refleja además la enmienda que hemos presentado a su proposición no de ley

no se diferencia de su iniciativa de origen no de la transada que tampoco

en aquella iniciativa de origen que nos trae eh bildu para debatir en esta cámara la única novedad que entra fue su eslogan de la anterior campaña electoral

no me voy a repetir porque me van a considerar ustedes cansina en por qué nosotros no apoyábamos eso eso ha decaído y volvemos a traer no sé cuántos puntos que por cierto

que tienen su cuestión viene recogido literalmente todo lo que ya está en el acuerdo anterior ni una sola novedad

y dicen que esto es para profundizar y concretar yo no lo creo

señora kortajarena que estábamos en la misma onda yo visto el devenir de su grupo

en qué onda están ustedes si en la de la preocupación real por quienes son más vulnerables o en la de eslogan de campaña permanente ustedes deberán explicar por qué

el porqué de congelar y descongelar iniciativas según sus necesidades porque igualmente los desempleados es igual que les ocupan pero no

finalizo con una cuestión y es que estamos convencidos de que nosotros pactamos entonces buenos mimbres para el desarrollo de políticas públicas efectivas que dan oportunidades

en lanbide a primeros de este mes y que hagan ustedes o se vayan a leer también la evolución del paro

y podrán ver que la tasa interanual de septiembre a septiembre ha supuesto un decremento del doce coma cinco por ciento del paro de larga duración

puede ser poco sí pero es probable que tenga que ver con esa dirección que acordamos todos y que hoy ustedes han dado por finiquitada nosotros fuimos capaces de llegar a un acuerdo en junio porque creíamos compartir esa sincera preocupación y esa sincera ocupación del colectivo me equivoqué

lamento profundamente que eso haya sido así y finalizo regresando al escepticismo

y voluntad real de llegar al acuerdo hoy a esa actitud y esa voluntad

tenemos capacidad de llegar a otro tipo de acuerdos con otro tipo de agentes para otro tipo de cuestiones y entonces no interesa mantener acuerdos unánimes eskerrik asko

egoera larri honetan sin duda es una preocupación compartida por todas y todos aquí reflejo asimismo

en la sociedad a la que representamos una cuestión previa sobre este importante acuerdo o sea sobre este importante tema y antes se decía tenemos hoy

del dieciocho acuerdo unánime antes del acuerdo del siete de junio del dos mil dieciocho la señora kortajarena en su legítima función

a este gobierno planteó una serie de iniciativas ella misma se ha referido a ellas como sus intentos una interpelación que se sustanció el diecisiete de marzo

su consecuente moción que se debatió el nueve de noviembre del diecisiete en la que usted acuerda con elkarrekin podemos pero termina aprobándose nuestra enmienda a la totalidad vuelve a presentar proposición no de ley el dos de febrero del dieciocho que usted lleva a debate en pleno el siete de junio cuando observo el detalle su ejercicio de impulso al gobierno

a hacerle un doble reconocimiento por un lado reconozco su perseverancia su actitud de constancia en la consecución de sus objetivos

no se lo recrimino todo lo contrario se lo reconozco por otro

que valoro muy positivamente gran parte del diagnóstico y las medidas que usted plantea si bien solo las comparto en parte pero como decía la señora castelo en aquel debate en el que yo no estuve no estamos tan desalineados quid pro quo

no le quiero engañar en gran medida aún siendo sinceramente cierto este reconocimiento interno lo hago público porque usted en junio del pasado año reconoció y no puso duda

creo constatable que usted perseveró entonces en la utilización del diálogo y como dice el lehendakari creo que usted dialogó con voluntad de acuerdo y consiguieron

y usted estaba muy contenta como ya se ha dicho aquí hoy estamos muy contentos porque efectivamente nuevamente la mayoría de esta cámara se suma a esta necesidad

nos lo dejaba claro además de la satisfacción nos lo dejaba claro a la señora castelo por aclarar una cosita decía por aclarar una cosita la posibilidad de este acuerdo la hemos ofrecido nosotras perfecto su acuerdo también de todos y todas

terminaba el debate con la segunda intervención de la señora llanos desde su escaño y decía la señora llanos y dentro de un año

y ella misma se contestaba dentro de un año tendremos que ver que las acciones se mejoran y tendremos que ver que mejoran los índices de los y las paradas de larga duración de acuerdo no está la señora llanos

de acuerdo señora llanos seguimiento y valoración totalmente de acuerdo hagámoslo medidas puestas en marcha atendiendo al acuerdo datos punto primero del acuerdo referido al desarrollo de medidas específicas que sirvan como elemento de choque para atender correctamente a las personas desempleadas de larga duración que dice el acuerdo

impulso en planes comarcales y locales acciones locales de promoción de empleo inserción laboral de personas desempleadas de larga duración todo el

todas estas iniciativas son acciones nuevas puestas en marcha para poder dar respuesta al acuerdo adoptado el siete de junio punto segundo del acuerdo contar con un asesoramiento de personas expertas y promover la participación de diferentes agentes

asesoramiento de personas expertas promover la participación de distintos agentes evaluación intermedia de la estrategia vasca de empleo con sus enlaces

bucear un poco seguimiento de los planes operativos anuales colaboración con la universidad pública vasca que aquí se ha comentado también

y habitualmente y de manera periódica

a través de el punto tercero del acuerdo hacía referencia

un encargo o un deber al gobierno era un compromiso para esta cámara resultados señora llanos segunda parte de su esquema resultados índices a modo de resumen en la

una fuerte disminución del colectivo de larga duración con un decremento del doce coma cinco por ciento mientras que el de corta duración disminuye un dos coma dieciséis por ciento este buen comportamiento del paro de larga duración es una excelente noticia ya que es un indicador de que la recuperación económica también

resumen del seguimiento y valoración señora llanos se han implantado medidas con importante calado económico y estas medidas en el corto medio plazo que es donde estamos están obteniendo excelentes resultados resumen del resumen

el gobierno vasco está cumpliendo el acuerdo parlamentario del siete de junio el gobierno vasco el departamento de empleo y políticas sociales

pero yo me pregunto del acuerdo del siete de junio solo derivan obligaciones para el gobierno vasco nosotras y nosotros no tenemos ninguna obligación las formaciones políticas que ocupamos estos escaños no tentemos la obligación de hacer seguimiento y valoración de este acuerdo no tenemos la obligación de hacer el control en el cumplimiento de este acuerdo

esta iniciativa el uno de febrero del diecinueve no parece en principio mucho tiempo para implementar medidas de este calado aunque es posible que el gobierno ya estuviese implementando estas medidas y en ese periodo

a febrero del diecinueve realiza usted alguna pregunta al gobierno antes de presentar esta proposición no de ley realiza usted esa función de control

no no realiza ninguna pregunta al gobierno para conocer si las medidas del acuerdo se están implementando hemos seguido nos decía hoy muy de cerca esta cuestión hombre de cerca de cerca

no y nos dice usted en su iniciativa y usted mismo nos lo dice en la justificación de su proposición no de ley

le parece riguroso no preguntar al gobierno que es el principal instado en el acuerdo y en base a unos datos datos ajenos al gobierno y que usted misma considera que no son novedosos plantear un posible nuevo acuerdo

poner en marcha el uno de febrero esta iniciativa que hoy debatimos y ocho meses después

preguntar al gobierno sobre esta cuestión no soy muy de dichos pero ese de poner el carro delante de los bueyes a usted en este caso le encaja perfectamente

una cosita como dice usted otra pregunta sobre el propio acuerdo

le parece responsable devaluar romper con esta iniciativa un acuerdo unánime

obteniendo resultados que hoy sabemos que los está obteniendo

no entiendo lo que no entiendo es que fuese tan perseverante para conseguir aquel acuerdo su acuerdo sea tan poco rigurosa para preocuparse por su materialización

para mantener para cumplir ese acuerdo no la entiendo

como considero que el trabajo parlamentario no es un juego a mí solo me queda una salida seguir cumpliendo el acuerdo unánime su acuerdo

perseverar en el acuerdo por ello como ya ha anunciado la señora castelo nuestra enmienda de totalidad se resume en reafirmamos en aquel acuerdo su

muchas gracias señora presidenta señor azpiazu señorías buenos días a todos le agradezco profundamente que esté para que traslade a sus compañeros de gobierno

en la cámara las ideas que estamos debatiendo sobre un tema que sé perfectamente que a usted

totales que llevan más de un año en el desempleo muchas de ellas más de la mitad llevaban más de dos años

teniendo en cuenta que la mayoría de ellos aparte de parados de larga duración son personas de más de cuarenta y cinco años

vamos a poner un número más bajo cincuenta y nueve mil familias las afectadas

una de los miembros de la familia está en desempleo en muchos casos aunque no desconozca el dato son todos los miembros los que están en desempleo es el único

que tiene esa familia que las cosas han mejorado desde los datos de agosto señor

una sola de esas personas que haya encontrado trabajo considero que ya tenemos un éxito necesitamos sesenta mil éxitos tenemos uno vale o tenemos mil fenomenal

más es más yo les pediría a ustedes que intenten ir a por cien mil éxitos más por si acaso no se consiguieran todos

y ese asunto que tanto nos preocupa a todos yo sinceramente creo que la parte importante de este debate no es el tiempo que llevaba en la nevera la iniciativa que ya lo debatimos

que tenemos un acuerdo de junio de dos mil dieciocho que se está rompiendo el acuerdo y que ya estamos haciendo cosas no no lo importante son las cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos personas

y como esas personas son importantes a mí no me importaría que la semana que viene volviéramos a hablar de esas personas y que pongamos todos encima de la mesa ideas no quieren ustedes votar la iniciativa pues no la voten no pasa absolutamente nada bueno lo digo yo que la iniciativa no es mía igual la señora kortajarena tiene otra opinión

el marco en el que estábamos trabajando junio de dos mil dieciocho y con los datos del diecisiete no es el mismo que tenemos ahora

acaba de saltarme de estas noticias que te saltan al ordenador de última hora y es una pena que el señor arriola haya salido y nos lo podría corroborar que

si la venta de pisos cae un veintinueve por ciento señor azpiazu usted me dará la razón eso significa que algo no está yendo bien

es que algo no funciona y usted mañana tiene un consejo vasco de finanzas

no son precisamente muy positivas ya nos lo contará

proyecto de presupuestos con medidas encima de la mesa yo ahí es donde quiero llegar al consenso que salga o no la iniciativa es lo de menos ustedes nota de ese problema que tenemos encima de la mesa porque la situación se va a poner mal algunos siguen viendo brotes verdes

y no quieren ver absolutamente nada pero lo cierto es que la situación va a ir a peor y quiénes de los que van a ir a peor quiénes van a ser posiblemente los más afectados pues los más vulnerables los parados de larga duración

responsabilidades familiares a sus espaldas en su mayoría mujeres es un porcentaje nada igualitario la verdad en ese colectivo

si hay un enfriamiento económico recesión crisis llámenlo como quieran son

que haya usted ya en este segundo punto del orden del día elevado el tono de su grupo y volver a ser una cámara educada porque el comienzo me ha parecido en fin

pero le agradezco mucho que vuelva a elevar el tono señor aiartza yo sé que las medidas

en este tema del que estamos hablando los planes

necesitan un tiempo para ponerse en marcha tomen medidas ya de antemano porque la situación se nos va a poner peor ustedes siempre nos han dicho que es el gobierno de las personas que por cierto qué pena que no esté el lehendakari algún día nos contará si este es el gobierno de las personas los anteriores de qué eran

dé la respuesta el gobierno de las personas vamos a centrarnos en las personas más vulnerables yo solamente mi grupo solamente puede apoyar el primer punto

y eh bildu porque los otros dos no acaban de convencerme el tercero porque considero que

política nuestros grupos están respaldados también en el congreso de los diputados y en el senado

pues habrá que presentar allí las iniciativas no veo sinceramente

el tema de la renta de garantía de ingresos no creo que sea el momento por supuesto que si es necesaria habrá que elevarla y estamos en pleno debate de la proposición

si algo me ha entristecido profundamente de la postura que defienden los dos grupos que soportan al gobierno es que terminan diciendo que

en la reforma de la renta de garantía de ingresos para dar cobertura a esas personas especialmente vulnerables yo

considero que eso es un insulto es decir al parado de larga duración que está en una situación crítica

que ya vamos a revisar la renta de garantía de ingresos para dar una solución a su problema me parece que efectivamente hay que hacerlo y hay que estar ahí pero que esa sea la oferta me parece tremendo al parado de larga duración lo que hay que decirle mire

para no vernos afectados por un enfriamiento de la economía para generar

no para que usted cobre una renta de garantía de ingresos durante más tiempo eso me ha parecido sinceramente un error un error por su parte colocarlo en su propuesta un insulto a las personas afectadas y por eso ese punto del acuerdo entre los dos grupos que han llegado a la transacción no lo vamos a aprobar pero sí que apoyaremos el primero y aunque no salga adelante les vuelvo a repetir por favor

tomen las medidas en los tiempos que vienen no van a ser precisamente muy positivos y estas medidas hay que tomarlas con tiempo

esos presupuestos que haya medidas directamente recogidas en el presupuesto pero medidas de las de verdad

en la información que nos remitieron ayer a última hora de la tarde pues sí el gobierno está haciendo todo esto hay partidas presupuestarias de tanto pero es que acabamos de salir de un debate donde el gobierno también se preocupa mucho

y nos enteraremos a finales del año que viene cuando nos traigan la ejecución presupuestaria

no me sirve que estén las partidas presupuestarias hay que utilizarlas hay que gastar ese dinero
y hay que preocuparse por esos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos dramas personales y familiares muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

guk ere goraipatu genuen hala da y hablaba de la actitud y la voluntad de los acuerdos pero

en tres ocasiones la situación de las paradas personas desempleadas de larga duración

no utilizando otro tipo de excusas como las que se utilizaron también en aquellos momentos de forma de ausencia de otras personas la iniciativa saliera adelante tres ocasiones actitud y voluntad de acuerdos y no sé si reiterativa es pesada

con una situación que es apremiante y que afecta y que tiene un impacto en la vida de las personas de muchísimas personas

a las que se les está terminando el tiempo

eta irakurri duzu bai neurri espezifiko bat badagoela y hablaba de los planes comarcales y hablaba incluso se mencionan planes de empleo juvenil de empleo juvenil para personas paradas de larga duración que yo mismo he reconocido que seguramente tendrán un impacto

pero aquí habíamos hablado de una estrategia diferenciada especializada y priorizada en las personas paradas de larga duración y de eso solamente hay una convocatoria que sale en septiembre del dos mil diecinueve en

para cien personas eso es lo que anuncia la consejera

la propia estrategia porque yo sí he buceado en los documentos que se mencionaban

esa estrategia ese documento es de julio del dos mil dieciocho no del dos mil diecinueve

que no se ha prestado especial atención a las personas de larga duración

hay que realizar una actuación especializada en este colectivo porque es el colectivo al que se le agota el tiempo y necesita actuaciones inmediatas ustedes

en esta iniciativa y además así creo que lo han expresado una especie de condena y de ruptura del anterior acuerdo cuando creo que ninguno de los grupos que firmamos la transacción y desde luego no el mío se ha retractado en la opinión de que aquel fuera un buen acuerdo o al menos un buen acuerdo en base de dónde partían las posiciones de unos

las posiciones de otros pero hoy se trae una iniciativa que va más allá de aquel acuerdo aquel acuerdo que se fundamentaba

acciones específicas para el colectivo de personas desempleadas de larga duración y hoy la transacción lo que propone es un plan de choque específico es decir algo que no es contrario a aquel acuerdo y a lo que el gobierno asegura que está haciendo sino que va más allá y que tiene que ver con las posiciones iniciales del debate original de mi grupo pero creo que también

esta cuestión a la cámara y lo cierto es que los grupos que apoyan al gobierno

muy poca intención de negociar nada y simplemente han querido escudarse en que había ya un acuerdo de hace un cierto tiempo es verdad que se podía haber esperado más

se podía haber esperado más pero también es verdad como he dicho en mi anterior intervención

muy potente que afecta de manera muy fuerte a la vida diaria de cerca de sesenta mil personas en este país es igualmente lícito

y traer esta iniciativa y ver si podemos acordar entre todos nuevas medidas y una reorientación pero los partidos que apoyan al gobierno en este caso no han querido hablar

de esta cuestión han querido refugiarse en que ya había un acuerdo anterior y que por lo tanto ya se estaba haciendo todo

alcanzado un acuerdo anterior se podía haber avanzado seguramente no hubiera sido todo

querido ya sabemos que la parte de las políticas pasivas y sobre todo la parte de la rgi se hubieran quedado fuera yo contaba con ello pero pensamos que se podría

y yo voy a defender esas dos cuestiones también que estaban incluidas porque son las cuestiones de alguna manera también diferenciadoras de lo que nosotros proponemos para esta cuestión y que son las más cuestionadas

yo comparto en cierta manera lo que ha dicho el señor ruiz de arbulo de que muy bien

es que tengan un empleo ojo no que tengan un empleo porque algunas de ellas cuando damos ayudas para la contratación pues consiguen un empleo

a hacer esto así no se deja de ser desempleado de larga duración pero es verdad que el empleo es la mejor solución yo lo comparto pero tenemos una realidad concreta ustedes

qué le décimos a un desempleado lo que le deberíamos poder decir es hemos generado hemos creado las políticas que van a permitir

dónde y cuándo al desempleado seguramente no le van a interesar nuestros debates y las cuestiones más o menos políticas le va a interesar dónde y cuándo pero la realidad es que son sesenta mil personas que en a corto plazo y lo he dicho antes ni siquiera con el plan de choque

no se va a resolver esta cuestión de una manera profunda vivimos en el sistema que vivimos y va a seguir habiendo desempleados

y una parte importante de esa cobertura además son las prestaciones por desempleo por eso nosotros pensamos que hay que hablar de ellas ya sé que son competencia de otra cámara ya sé que tenemos compañeros en aquellas cámaras para defender esto pero también me parece

que esta cámara en representación del pueblo vasco puede emitir opiniones y debería emitir una opinión sobre esto que está relacionada con la situación de las y los desempleados de larga

yo sí creo que es el momento de hacerlo porque creo que el momento pasó hace mucho tiempo

ad hoc para recortar la renta de garantía de ingresos no había

ningún argumento técnico real para defender aquel cambio se cambió el indicador

por primera vez de una manera más grande que en años anteriores y por lo tanto nosotros lo defendemos porque mucha de esta gente también depende de esto y estamos hablando además tanto en las prestaciones

estamos hablando de cuatrocientos de quinientos de seiscientos euros con eso no se vive en euskadi y por lo tanto me parece que es muy importante que cuando

en la iniciativa y en lo que salga de este parlamento aunque alguna de las partes sean declarativas porque no tenemos

la prestación saben lo que supone si aumenta la prestación o aumenta la cobertura

importante que cuando hablemos de políticas activas de empleo

si hablamos de desempleados hablemos también de las políticas pasivas y hablemos también de cuestiones como la rgi eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak

me dice la señora kortajarena que hemos salido a descalificar no hemos salido a calificar con perspectiva del tiempo

su primera iniciativa veinte de marzo del diecisiete al congelador hasta noviembre del diecisiete

la de noviembre ustedes saben y ahí discutimos también en esta tribuna por qué se llegó o no a un acuerdo febrero del diecinueve nueva iniciativa

necesitan una respuesta inmediata se les acaba el tiempo es necesario salir al rescate

seguramente claro no se enrede usted en cuestiones formales entre al contenido si es que al contenido

si es que el contenido de lo que ustedes me traen hoy aquí ya está completamente en el acuerdo de junio del dieciocho por qué tengo que ratificar algo que ya he aprobado

lo metemos en una página aparte le ponemos un título plan de choque las mismas medidas y entonces ya está

es que no funciona así la cosa y no funciona además cuando hacen trampa en la respuesta cuando aquí dicen no queremos jugar al mus

y no se quiere pero aquí se habló de utilizar los planes comarcales y los planes de empleo y no es para que un desempleado de larga duración que por cierto

que vaya con mayores de cincuenta y cuatro o con menores de treinta o con mujeres o con discapacitados es que el colectivo

y cuando incentivas la contratación o especificas en los planes de empleo que vayan a mayores de cuarenta y cinco estás incentivando su contratación

que lo que se intenta desde la protección de un empleo en un plan de empleo es exactamente dar esa experiencia que igual ellos no pueden tener en una empresa normal porque es verdad que el gobierno

a que se incentiven esas oportunidades pero quien crea las oportunidades son las empresas el mercado la coyuntura

el señor ruiz de arbulo por tanto

por eso no ha habido un solo esfuerzo en este momento de llegar a un acuerdo ni había voluntad

una desde la posposición de la semana pasada a esta una ayer a última hora yo me he enterado que había transaccional hoy cuando he llegado al parlamento eso ha sido el interés la otra vez estuvimos trabajando aquí no también es cierto

los datos dicen que la tasa interanual septiembre del dieciocho septiembre del diecinueve acuerdo de junio del dieciocho ha bajado en un doce coma cinco el desempleo de larga duración y decían aquí alguien que ha salido me dice se necesita un tiempo para poner en marcha y que den resultados se han puesto en marcha sí

es que hemos dejado una iniciativa diez meses y la traemos hoy

me enredo porque en medidas ninguna y en proponer cosas nuevas de ellos nada de ustedes ni antes ni ahora porque no enmiendan se van a la situación facilona de intervenir los últimos y no proponer una sola idea yo sí que hay una cuestión que ha dicho

nuevos a este parlamento con acciones nuevas y no a tener que refritear las intervenciones que ya hemos hecho en cuatro ocasiones

cambiar la perspectiva de una iniciativa que no trae nada nuevo cuando hay resultados cuando el gobierno está comprometido con el cumplimiento de una proposición no de ley sacada por unanimidad simplemente por el hecho de airear en un momento determinado porque interesa a un grupo político y los demás le dan cobertura la situación de un colectivo que desde luego

ruiz de arbulo hablaba de la consejera y le ponía un encargo al sailburu azpiazu a mí me consta que la consejera está en la conferencia sectorial de servicios sociales en madrid

supongo que lo habrá conseguido vernos en directo hablaba usted del éxito bien

una persona es un éxito sin ninguna duda y el objetivo de este gobierno es

todos esos éxitos posibles sin ninguna duda el debate de hoy no era ese el debate de hoy era acuerdo

y si esas medidas como decía su compañera la señora llanos si esas medidas se han puesto efectivamente en marcha con qué dotación económica y el impacto de esas medidas que hemos visto que está dando resultado ese era el debate ese era el debate para nosotros otra cosa es que se haya querido tergiversar el debate señor hernández y en esta línea decía usted se podía haber esperado más por supuesto que sí

mire aquí se podía haber esperado más por supuesto que sí

para atender al detalle de todas y cada una de esas medidas concretas

que están generando que sabemos además que es positivo a eso se debería haber esperado pero no nos mire a nosotros mire para aquí que el debate lo ha traído

algunas conclusiones o algo previo la descalificación personal el argumento ad hominen ese de álvarez de toledo yo aquí no lo he visto señora kortajarena yo aquí no he escuchado ninguna descalificación personal

yo mantengo que no hay rigor en su proposición no de ley no hay rigor y creo

creo que esta iniciativa y esto ya es una valoración nació muerta usted la congeló nació muerta porque usted no realizó esas funciones usted que

en aquellos momentos que yo le he dicho preguntas concretas al gobierno que era

y eso está probado que le recordemos eso eso no es una descalificación personal y al descongelar esta iniciativa

decía hombre yo creo que hay que ser un poco más riguroso también cómo hacemos ciertas valoraciones

avanza de forma positiva en la consecución de estas cuestiones parados de larga duración es la coyuntura

de forma positiva es culpa del gobierno hombre creo que tenemos que centrarnos en las medidas y los efectos que con ellas estamos consiguiendo sobre la responsabilidad

iniciativa por qué porque usted parte de unos datos erróneos porque no preguntó al gobierno

parte de unos datos erróneos con lo cual el diagnóstico es erróneo sobre la intención

compartimos que el colectivo de personas paradas de larga duración

medidas concretas que son las que se han puesto en marcha para que no se cronifiquen en esta grave situación quizás me equivoqué

compartíamos junio del dos mil dieciocho me pasa como a la señora castelo la intención señora kortajarena

cuando en febrero de este año presenta esta iniciativa qué le impulsa

trampa parlamentaria la forma nos hablaba de la forma

porque estas formas no son aceptables la forma es importantísima y afecta en el contenido del debate

usted sabrá lo que le impulsa para usted queda en cualquier caso no es la preocupación por las personas paradas

su rigor y su responsabilidad en el excelente cumplimiento del acuerdo que se ha aprobado además del acierto que se materializa señora llanos como usted decía

ustedes sí que se preocupan por las personas eskerrik asko aiartza jauna euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

y desde luego nada más lejos de nuestra intención y de verdad

tergiversar este debate en absoluto yo he puesto una realidad encima de la mesa una realidad con unos números unos números que están mejorando les he dado la enhorabuena pero les he dicho que las cuestiones es que no me acuerdo lo del latín lo llevo fatal pero había una cláusula que se decía cuando yo estudiaba la carrera que era estando las cosas como están pues los acuerdo tienen

es que las cosas han cambiado es que las cosas están cambiando y están cambiando muy rápidamente y las cosas están cambiando a mal los marcos

que no nos tenemos que engañar el marco ha modificado los acuerdos las medidas que se tomaron ya sé que es hace poco tiempo hace un año no son suficientes hay que mejorarlas y hay que estar preparados para dar una respuesta inmediata

para que como dice usted el gobierno de las personas sea el de todas las personas no el de las personas que tienen ocupación no el de los funcionarios no el de los parados

reducir un quince por ciento el índice de personas desempleadas no preocúpense

de los más desvalidos de los más vulnerables de los mayores de cuarenta y cinco años de los que llevan más de un año o de dos en desempleo y que el futuro es muy negro de eso se tienen que preocupar demuestren que ese es el gobierno

tomen las medidas inmediatamente si no pedimos otra cosa podemos estar de acuerdo o no de acuerdo en el punto segundo en el apartado tres bien vale pero traslademos

a esa realidad y que el parlamento es consciente de lo que nos viene encima y que por eso se van a tomar medidas y se van a hacer las cosas y que no sirve

presentar unos planes fantásticos estupendos dotados presupuestariamente si eso luego no nos lleva a reducir

de ese grupo de vascos en un porcentaje de un treinta o de un cuarenta por ciento que es lo que nos gustaría a todos no se ha conseguido bueno pues igual es que las medidas no eran las óptimas mejorémoslas y como las cosas han cambiado mejorémoslas y estemos preparados para efectivamente dar una solución a los ciudadanos

esa era simplemente mi intención desde luego no tergiversar ningún debate muchas gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna

sí gracias buenos días de nuevo señora presidenta lehendakari consejeros consejera bien

consejera de salud sobre su valoración de la exclusión de las farmacias de la orden

que regulaba los programas de apoyo a la modernización de los establecimientos comerciales

por esa orden quedaban excluidas era el segundo año hasta hace dos años

disfrutaban estaban eran beneficiarias como comercios que son de los apoyos del departamento de comercio y de las ayudas a la modernización de los establecimientos comerciales sin embargo en estos dos últimos años la orden

en concreto cuando regula la orden a los beneficiarios dice claramente que no serán beneficiarias de las ayudas reguladas

y farmacias como comercio al por menor de medicamentos productos sanitarios y de higiene personal es decir algo que es

desde nuestro punto de vista y además en la interpelación no quedó nada claro el porqué de esa exclusión

salvo que no era competencia del departamento de salud

comercio consumo y turismo y que era su decisión pero los elementos de fondo

no en absoluto para este grupo parlamentario y yo creo que fueron más bien

de grupos y desde luego desde nuestro punto de vista no compartimos esa decisión y por eso hemos presentado esta moción esta moción para

las órdenes de apoyo al comercio y a la modernización de los mismos además las farmacias son

de establecimientos comerciales de proximidad y de estrecha vinculación con el cliente con los ciudadanos para muchas cosas aparte de para venderles medicamentos y otros productos para información

para consultas técnicas es decir son un comercio estrechamente vinculado al cliente de una manera esencial es decir en los pueblos en las ciudades en todos los sitio es decir es un comercio habitual constante

vimos el pasado martes en la comisión de salud que los representantes del consejo de farmacéuticos de euskadi que comparecieron en la misma

importantes cuestiones y lamentaron la exclusión de la farmacia comunitaria de los programas de ayudas al comercio y decían

les preguntábamos qué les dicen o cuál es la justificación bueno pues que

que ya les han dado dinero en otros programas anteriores

y desde luego pues bueno argumentos que estaban funcionando por ahí pero no se entienden y desde luego

esta exclusión de los dos últimos años y menos por razones tan peregrinas como esa que piden mucho o que ya

un comercio que está en constante evolución y que necesita permanentemente de esa modernización

igual por eso mismo lo que no se les puede es excluir entendemos nosotros además las oficinas de farmacia son además de comercios son otra cosa importante

de alguna manera son centros de interés público son centros socio sanitarios de información sanitaria de orientación en la salud

congratulamos de ellos porque forman parte de la colaboración público privada y de los acuerdos con los colegios y farmacéuticas los colegios de farmacias hacen con las administraciones públicas hasta tal punto que son esenciales todas esas

la de centros de interés público que son son esenciales y

en relación con sus obligaciones con los horarios con la nocturnidad con muchas obligaciones especialmente características de las farmacias

en ese sentido razón de más para no comprender la exclusión de la orden del gobierno vasco además

en modernización en informatización en robotización en comercialización es decir en empleo

el ejemplar proceso de implantación de la receta electrónica en el conjunto de españa que luego ha ido seguido de muchas otras inversiones que lo hemos podido comprobar todos y cada uno de nosotros

farmacias que vemos en nuevas inversiones desarrollos informáticos tecnológicos de infraestructuras robotización es decir lo hemos visto lo comprobamos día a día y ha sido un esfuerzo importante por la profesionalización

además en ciudades lo han hecho en nuestros pueblos y en toda la geografía

lo van a seguir haciendo por exigencias europeas incluso

porque va a ser necesario ampliar la capacidad de actuación de las farmacias en su labor

como ejemplar también ha sido el tiempo de colaboración público privada a la que los colegios de farmacéuticos de álava bizkaia y gipuzkoa han estado siempre abiertos con la administración

de iniciativas a través de instrumentos jurídicos pero a través de una colaboración natural y que ha funcionado muy bien y que todos hemos sido testigos de la misma

y eso es lo que tendría que seguir funcionando y ahora parece que algo entra en crisis y como mejor lo hacen es además profesionalizando sus oficinas

el pasado día ocho en la comisión el número de farmacéuticos por farmacia es de tres coma tres de media en el país vasco superior al del conjunto de españa que es del dos coma cuatro o los más avanzados países de la unión europea también nos lo recordaban el otro día aquí tres coma tres farmacéuticos a parte de otro tipo de personas otro personal auxiliar en las farmacias sin contar

como actividad comercial es decir se profesionaliza la oficina de farmacia cada día más se genera empleo en las ochocientos treinta y cuatro farmacias que hay en euskadi y sin embargo eso no merece una consideración comercial para el gobierno vasco

y sin contar como decía antes con las inversiones por venir

de adaptar la receta electrónica a países de la unión europea

es decir más exigencias más complejidades de gestión internacional los idiomas la adaptación a nuevas normativas

y la oficina de farmacia en su labor comercial en su labor de intermediación con los clientes es decir

es centro sociosanitario es comercio privado de interés público dentro de poco va a ser comercio privado de interés público internacional

cómo se les priva de las ayudas del departamento de comercio y por ello es lo que pedimos que en la próxima

después de dos años de incomprensible rechazo

están preocupados en relación con esa exclusión no la entienden hemos visto que tampoco se nos ha explicado a nosotros ni a ellos el porqué de ese rechazo entendemos que

es injustificado y por eso hemos presentado la moción

a que reintegre a las oficinas de farmacia como entidades

en las órdenes del departamento de turismo comercio y consumo en las que se regulan y convocan los programas de apoyo a la modernización de establecimientos comerciales

iniciativa algunos ya me han dicho que la van a rechazar no lo entendemos no lo entendemos

explicarán ahora en cualquier caso si la rechazan pues estableceremos la vía

de lo que el departamento de comercio y consumo ha abandonado pero bueno lo intentaremos por la vía que podamos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

explicación de voto es una pnl

gracias presidenta pero el grupo socialista ni comparte la decisión de la mesa y es la primera vez que nos encontramos en esta situación
no acabo de entender por qué me veo obligada a entrar en el debate pero bueno si no quieres no entres en el debate puedes votar y no entrar en el debate si no

pues hay lo que hay ese es el turno ah bueno pues nada señor barrio le comento

no vamos a apoyar su propuesta y vaya por delante el reconocimiento de los socialistas vascos a la labor que ejercen los y las profesionales en las oficinas de farmacia como agentes integrantes de pleno derecho

de salud mire dos son los motivos por los que no hemos apoyado el reintegro de las oficinas de farmacia como beneficiarias del programa de ayudas a la modernización de los establecimientos comerciales primero porque su pretensión es contraria a la política de gestión del programa de ayudas de modernización

porque su propuesta distorsiona los objetivos que se fijaron

del plan director de comercio y la reasignación de recursos que también se realizó

lo que supuso un cambio de criterios de los programas con la finalidad

y en segundo lugar no apoyamos su propuesta por las características

de las oficinas de farmacia en euskadi porque están reguladas explícitamente por la ley de ordenación farmacéutica y al estar excluidas de la famosa

esto les proporciona una ventaja competitiva clara frente al resto del sector comercial porque su actividad principal

como sí pasa con el resto del sector comercial que no son

el programa de ayudas a la modernización de los establecimientos comerciales en el contexto de las políticas del departamento de turismo comercio y consumo obedece a la necesidad de responder

ante el proceso de reconversión y modernización del pequeño comercio porque el pequeño comercio como actividad económica está afrontando cambios sustanciales para su existencia presente y futura cambios en el desarrollo tecnológico

los retos digitales nuevos entornos de competencia global

a gestionar con márgenes que se estrechan progresivamente y porque se están desarrollando nuevas tendencias sociales y de comportamiento de las personas consumidoras que modifican y están modificando sus hábitos de consumo

que gasta de otra manera y que demanda además de productos servicios prestados por el comercio

con las oficinas de farmacia y su actividad principal por eso los programas de ayudas al comercio tienen como objetivo fundamental promover la mejora competitiva del sector comercial

y facilitando su renovación los nuevos criterios introducidos para conseguir una mayor eficacia del programa son la consolidación de la empresa de al menos tres años la inversión tecnológica por los softwares de gestión o páginas webs para la venta la adaptación a las nuevas tecnologías las bonificaciones al empleo indefinido

o incentivos incluso a la sucesión empresarial asuntos todos ellos que inciden directamente

que se encuentra realizando con exclusividad una actividad exclusivamente mercado situación que no es la de las oficinas de farmacia porque la oficina de farmacia en cambio realiza una actividad principal como agente de salud regulada legalmente y exenta de la liberalización de los servicios de comercio interior

excluye los servicios sanitarios y farmacéuticos de la liberalización que aplica para el resto de los servicios de comercio interior y por tanto las oficinas de farmacia no están jugando ni juegan con las mismas reglas ni tienen las mismas necesidades de adaptación que tienen el resto del sector del pequeño comercio en esa economía de libre mercado y de libre competencia la gran diferencia señor barrio

es que su actividad está regulada por la ley de ordenación farmacéutica de mil novecientos noventa y cuatro y que los criterios para el establecimiento de farmacias son criterios técnicos sanitarios cuya regulación avalada por europa de forma excepcional en toda la actividad de comercio interior limita de forma excepcional de la libre competencia su libre establecimiento y hasta su actividad

esa es la ventaja competitiva de las oficinas de farmacia

del sector del pequeño comercio y lleva a la administración pública a intervenir

en ese programa de ayudas a la modernización de establecimientos comerciales concluyendo

no son comercios al uso su actividad principal de servicios farmacéuticos les otorga una ventaja competitiva a través de la normativa

en vigor que no tiene el resto del sector del pequeño comercio

las acciones y los programas de apoyo al comercio del gobierno vasco deben priorizar los intereses generales de la mayor parte de un sector

en un escenario además muy complejo dificultoso de reconversión y que está suponiendo una clara desventaja

que aunque hayan visto disminuida su rentabilidad nos lo decía el presidente del consejo farmacéutico de euskadi por la aminoración de ingresos

sí ven un futuro mejor en esa rentabilidad en los servicios sociales y clínicos relacionados con la salud nada más y gracias

mozio horren kontra bozkatuko dugu la orden del departamento de comercio turismo y consumo

la orden de ayudas para la renovación de infraestructuras y de herramientas de gestión en los comercios en su artículo tres no excluye solamente a las farmacias excluye

excluye el comercio al por mayor y al por menor tanto de combustibles como de vehículos es decir son varias las actividades que están excluidas

esa exclusión de diversos sectores es potestativa del gobierno vasco ya ha sido explicada en la intervención anterior también pero es potestativa del gobierno vasco y si a un sector considera que le corresponde estar dentro

de esas subvenciones más allá de eso y dejando claro que no existe una discriminación

correspondientes administrativas o administrativo legales lo que sí podríamos plantearnos es si es correcto o no que las farmacias sean uno de los sectores excluidos

es un sector regulado es decir no se pueden poner en una calle tantas farmacias como se deseen y sí se pueden poner tantas panaderías como se deseen porque hay esa libertad esa libre competencia de alguna manera

y al ser un sector regulado obviamente no compiten en las mismas condiciones que el resto de comercios que sí pueden ser objeto de esas ayudas

tengo que darle parcialmente la razón al señor barrio que las farmacias no tienen un

también tiene un objetivo socio sanitario importante y fundamental pero en ese caso no correspondería este debate aquí en este debate respecto a las ayudas del departamento de comercio sino cómo desde el departamento de salud se puede ayudar a las farmacias a hacer mejor esa labor y la realidad es que

el consejo de farmacéuticos del país vasco recibió dos millónes de euros exclusivamente para las farmacias vascas para adaptar sus sistemas de gestión por lo tanto

y es verdad que el departamento de salud tiene sus propias líneas podríamos hablar es cierto de que la crisis económica en ciernes ya

y que ya puede haber farmacias y de hecho las hay que estén viendo reducidas sus cifras de ventas como también hay panaderías y tintorerías y pescaderías todo el comercio está sufriendo y no creo que las farmacias sean el sector que más está sufriendo

valorar esta cuestión lo que yo entiendo es que no es este el momento

respecto de farmacias de barrio o farmacias rurales que sí tienen un componente socio sanitario que sí tienen un componente social más importante que otras

y por lo tanto entendemos que respetando el derecho del señor barrio a presentar la moción desde luego nuestro grupo
no la va a apoyar gracias eskerrik asko becerra jauna eh bildu taldearen ordezkaria

que las oficinas de farmacia realizan en los programas de adherencia de tratamientos en el seguimiento fármaco terapéutico

en la prevención del vih y otras enfermedades de transmisión sexual es justo reconocer

realizan también en el ámbito socio sanitario como ha dicho el señor becerra por ejemplo en cuanto al uso de medicación con las personas atendidas en los servicios de ayuda a domicilio horrez gain

ahora hagamos el ejercicio a mí me gusta ser bastante clara y vamos a hacer un ejercicio de visualizar un poco lo que vemos alrededor en cuanto a comercios locales pequeños de esos de proximidad que decía el señor barrio en nuestros barrios

ciudades no podrán negar que hay menos comercio pequeño comercio no podrán negar que desaparecen cada vez más

esa droguería o que las que se mantienen se mantienen con muchas cuántos comercios de este tipo han desaparecido en sus barrios en nuestros barrios y ahora les propongo otra reflexión alguien conoce alguna oficina de farmacia

pues yo no conocen algún pequeño comercio de su barrio que tenga el mismo mostrador desde hace varias generaciones y no por gusto precisamente que esté a falta de modernizarse

yo sí cuántas oficinas de farmacia conocen en esa situación que estén a falta de un ordenador

a mano yo ninguna conocen alguna oficina de farmacia que necesite cambiar la imagen

profesional como dice esa orden yo ninguna

con poca población y que pueden tener comprometida su viabilidad

eso es cierto esas oficinas llamadas farmacias vec pero es que también reciben una compensación extraeconómica anual por parte del departamento de salud

que las representantes de los colegios farmacéuticos en la comisión del martes aseguraron que por oficina de farmacia trabajan una media de tres coma tres farmacéuticos y farmacéuticas

otro tipo de profesionales con los que también cuentan auxiliares etcétera etcétera que es una buena noticia porque como bien ellos dijeron contribuyen a la creación de empleo

y que se fijen en ese pequeño comercio de su barrio o de su pueblo y díganme si la dueña o dueño de ese comercio se puede permitir ese nivel de contratación

bi milioi eta egun inplementazio hori osatuta dago los representantes de los colegios farmacéuticos en la comisión de salud anunciaron que tienen intención de ampliar la receta electrónica a otros ámbitos como recetas de servicios médicos privados de servicios veterinarios

barrio que no sea esa la necesidad de modernización

comparte y como negocios privados que son pues nosotras también entendemos que desde los colegios soliciten acceder a esa línea de subvenciones es normal pero

va a apoyar esta iniciativa del grupo popular

son similares a los que ya hemos escuchado y

lo voy a hacer sin ninguna duda estamos hablando de un programa que el departamento de comercio consumo y turismo viene poniendo en marcha desde hace ya unos cuantos años para la modernización de los establecimientos comerciales

adaptaciones que se van incorporando a lo largo de los diferentes

es pertinente a fin de que realmente se adecuen a las nuevas realidades a las que el comercio se tiene que ir enfrentando y sobre todo a fin de centrar el foco

en este sentido el departamento de comercio consumo y turismo hizo un análisis de la situación

la señora corcuera yo no me voy a extender a repetir otra vez los mismos argumentos por no alargarme demasiado en todo caso

responden a parámetros diferentes a los del comercio de proximidad

son algo más que el típico local comercial su situación desde luego tiene poco

para abrir una farmacia se requieren una serie de requisitos muy específicos

se trata de un sector el sector de las farmacias como décimos sujeto a una regulación

público del servicio sanitario que desde las mismas se ofrece y estas exigencias hacen que la oficina de farmacia para que puedan prestar un adecuado servicio de proximidad a la ciudadanía necesariamente sean parte del comercio

un sector sujeto a una normativa concreta a una regulación específica a la que no está sujeto el resto de establecimientos comerciales lo que limita a la competencia

tengan permítanme decirlo una cierta ventaja competitiva respecto

de libre mercado una realidad por tanto muy diferente

llamado comercio de proximidad que es el que se prioriza en esta orden de ayudas sobre la que estamos debatiendo pero como apuntaba anteriormente insisto con cualquier programa desarrollado por parte de la administración pública

a fin de posibilitar una adecuada redistribución de los recursos públicos que permitan incidir en quien más lo necesita en función de la coyuntura concreta en todo caso

nuestro grupo reconoce la gran labor el gran papel que hacen las farmacias en tanto que contribuyen

sin ninguna duda son mucho más que un establecimiento comercial al uso y sin duda cuentan y seguirán contando con nuestro apoyo claramente y no solo con nuestro apoyo un apoyo claro por parte de la administración pública por parte del gobierno vasco

trabajando y colaborando estrechamente con los colegios oficiales de farmacéuticos ha mostrado un apoyo evidente

lo han dicho insistimos muchos años de colaboración de trabajo conjunto en la puesta en marcha de diferentes programas de atención farmacéutica de hecho en la comisión del pasado día ocho a la que también se ha hecho referencia aquí se nos trasladó desde los propios colegios oficiales de farmacéuticos el claro reconocimiento por este trabajo conjunto

reciben un trabajo compartido que como décimos lleva tiempo y se sigue además en este sentido como digo no hay ninguna duda de ese apoyo que hay se ha hecho también referencia aquí de ayudas incluso que ha habido en momentos con el tema de la implantación de la receta electrónica ayudas

de las farmacias vec no voy a volver a repetir los argumentos en todo caso yo creo que son actuaciones

el apoyo y el reconocimiento claro que se hace desde el gobierno

realizan y por ese agente activo importante además en el propio sistema sanitario bueno yo termino no voy a extenderme insisto

no va a apoyar esta moción que ha presentado el grupo popular

creemos que el colectivo de establecimientos farmacéuticos en este momento no se encuentra en una situación de especial

los poderes públicos debemos de contribuir con los recursos que tenemos a nuestro alcance a la mejora y el desarrollo de aquellos que presentan problemas de

es un sector que está padeciendo situaciones muy complicadas con situaciones

los cambios de uso que tenemos las personas en cuanto a

cuestiones que están haciendo que estén pasando momentos complejos y complicados y en ese sentido no podemos obviar que el espíritu de estas ayudas a la modernización de establecimientos comerciales es priorizar los mismos precisamente a aquellos comercios que verdaderamente

su propia subsistencia eskerrik asko eskerrik asko otalora

muchas gracias presidenta muy bien todos valoran las farmacias las oficinas de farmacia y los farmacéuticos y su labor pero les dejan fuera

la pinza de los cuatro grupos parlamentarios contra la iniciativa que presenta el partido popular

la pinza es la palabra de moda vamos a

le exime ni le deja fuera de ser un comercio en toda regla claro que sí

de que las farmacias forman parte de un sector regulado y hay que dejarles fuera de las ayudas del comercio

bolkestein eso se lo ha sacado usted porque le viene muy bien y desde luego no entendemos ni compartimos

lo que dice usted de contraria a la política de gestión de modernización de establecimientos comerciales es decir pues habrá que cambiar esa política porque vuelvo a decir las farmacias están consideradas como un comercio en toda regla un comercio de proximidad y dice porque hay que hacer más eficaces el comercio pues también a las farmacias porque eso es lo que se ha estado haciendo desde mil novecientos noventa y cuatro

efectivamente se han podido beneficiar y se van a tener que seguir beneficiando porque vuelvo a decir hay temas sobre la mesa muy importantes la oficina de farmacia señora corcuera también es pequeño comercio y también los márgenes de las

ya lo conoce las oficinas de farmacia dice usted que no son comercios al uso

porque usted bien sabe que las oficinas de farmacia expenden los medicamentos sí pues comercios de cosmética segura alimentación infantil

personal cuidados e higiene del bebé podología homeopatía parafarmacia

es que tienen unas características comerciales como el resto

en muchas de las dimensiones en las que operan en ese sentido pues no entendemos

dimensión comercial que tienen las farmacias quede fuera de las ayudas
y por eso lo reclamamos isiltasuna mesedez señor becerra también hablaba que

porque ha metido la farmacia no solo las farmacias están excluidas esta la venta de armas y la venta de coches

me compare la oficina de farmacia tradicional de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y algunas oficinas de farmacia se han cerrado algunos pueblos por ahí han tenido que cerrar y clausurar su oficina de farmacia y eso lo sabemos

compare usted esa exclusión porque no tiene sentido la oficina de farmacia y usted dice bueno es algo que el gobierno vasco dice y como dice el gobierno vasco nosotros

de regular y desde luego que va a ser necesario el apoyo en el futuro porque la receta electrónica

dos millónes de euros entre ochocientos treinta y cuatro farmacias son dos mil cuatrocientos euros bueno pues eso es

entendiendo ya sabemos que algunas farmacias han recibido más de dos mil cuatrocientos y otras menos pero no me parece una cantidad desorbitada

visualizar a las oficinas de farmacia y su modernización

establecimientos comerciales bueno afortunadamente se visualiza que las oficinas de farmacia expenden con unos ordenadores te dan ticket tienen un sistema

pero porque es una exigencia de la administración no porque la administración les de dinero para que hagan esas cosas sino porque es una exigencia de la administración y lo tienen que hacer igual otros comercios también se podrían modernizar también

es que tiene todas las características de los comercios además cumplen una función pública y un interés público

aunque no les den ayudas porque en estos dos últimos años no han tenido ayudas y han seguido

tienen que seguir expidiendo tickets de una manera concreta clara y diáfana para la información del consumidor y del cliente y eso lo hacen ellos no lo hacen con las ayudas y hay una cosa fundamental y con eso concluyo señora presidenta mire la comisión europea

europea desde el pasado diecisiete de junio los ciudadanos finlandeses ya podrán recoger los medicamentos en farmacias de estonia desde enero de este año lo podrán hacer en las boticas de croacia vale pero mire la intención es que para dos mil veintiuno

está compartiendo información por esa vía la unión europea para aplicar los criterios de dispensación a través de un programa

entre los que figura españa es decir ya para el dos mil veintiuno va a haber que hacer unas inversiones y unas adaptaciones y vuelvo a decir porque lo decía antes en materia de gestión internacional en materia de idiomas en materia de muchas cosas en relación con lo que tiene que ser una necesidad

de la administración y del departamento de comercio nosotros seguiremos intentando esta vez
al departamento de salud a que asuma una obligación que va a ser necesaria en los próximos años muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

presidenta en primer lugar reconocer que tenía razón

salir de esta cámara plenaria sabiendo algo más en segundo lugar respecto a lo que planteaba

el señor barrio mire yo entiendo la tozudez a veces verdad porque cuando uno está implicado pues tiene

yo creo que es usted plenamente consciente de cuál es la diferencia entre las oficinas de farmacia y los problemas que está padeciendo el sector del pequeño comercio cuáles son las diferencias la actividad principal de una oficina de farmacia está regulada por esa ley de ordenación farmacéutica de mil novecientos noventa y cuatro se ha hecho

dirigido especialmente a saber cómo se estaban cumpliendo los objetivos o no de ese plan director de comercio y aquella evaluación dio lugar a ese cambio de criterios entre ellos entre algunos de los programas al programa de modernización de establecimientos comerciales y en tercer lugar yo no me he inventado la directiva

porque la directiva de servicios señor barrio algo que a usted le ha parecido o

de este tema de las oficinas de farmacia porque la actividad de expender o de ofrecer servicios farmacéuticos y sanitarios que tienen como actividad principal las oficinas de farmacia es una actividad que no está liberalizada a través de esa directiva de servicio no está liberalizada de los servicios de comercio interior

sobre el resto del sector del pequeño comercio de la venta ambulante de todo lo que usted quiera todo el resto de servicios de comercio interior están sometidos a la libertad de mercado y a la liberalización de dichos servicios por esa directiva bolkestein por lo tanto no es que usted no entienda yo a usted le considero que tiene suficiente altura y

por lo tanto usted no quiere entender hoy no quería entender la posición de los cuatro grupos y no es que sea una pinza es que oiga pues a veces pasan estas cosas

lamento que no haya podido arreglarse

por otros caminos pero bueno supongo que usted hará otra iniciativa y que intentará que llegue a buen puerto muchas gracias eskerrik asko

que el sector farmacéutico tiene otras vías que no sean este parlamento para defender su postura y es

ahora sí que tienen otras vías el sector farmacéutico

del departamento de comercio a nuestro grupo sí nos resulta adecuado en esta ocasión no mantenemos entre usted y yo como se puede ver de hecho hubiéramos excluido incluso algún otro sector comercial pero bueno admitimos que la orden está así y que el sector que se sienta discriminado puede ir a los tribunales dicho esto hay que

aprobada en el parlamento europeo con los votos del grupo popular y del grupo socialista

eskerrik asko presidente anderea señor barrio efectivamente la farmacia

un servicio de proximidad a la ciudadanía en ese sentido lógicamente tiene que estar incluida en el entorno del comercio urbano pero asimilar o asemejar la farmacia a otro tipo de establecimiento comercial no sé

o ciudades dos tres veintiocho las que se quieran pues porque como hemos comentado antes la farmacia está sujeta a una normativa específica una regulación muy concreta y en ese sentido yo creo que todos somos

son diferentes respecto a otros sectores comerciales precisamente el que sea un sector regulado lo que hace es garantizar que no haya una proliferación desmesurada de oficinas de farmacia sin control les garantiza que no tengan competencia pero es que además usted nos ha dado una larga lista de productos distintos a los medicamente que se venden en las oficinas de farmacia relacionados con el cuidado

no seré yo ni mi grupo por supuesto quien dude de que eso esté bien y que sea conveniente que vendan este tipo

estos establecimientos las farmacias no olvidemos que se benefician de la exclusividad que les da precisamente ese carácter que tienen como oficina de farmacia en ese sentido quizá no sea el momento de que puedan ser beneficiarias

en establecimientos comerciales que funcionan en el libre mercado y que se encuentran

está orientada esta discriminación positiva que se hace en esta orden de ayudas de la que hemos debatido hoy eskerrik asko eskerrik asko otalora